egun on legebiltzarkide guztioi ere hoy vengo a presentarles la que espero sea la próxima ley denominada de aportaciones para el periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis y que como todos ustedes saben será la que

haría la número diez será una presentación breve porque es de sobra conocido el contenido del acuerdo

que definía la metodología para el cálculo de aportaciones ahora convertida en proyecto de ley por el gobierno vasco el veintisiete de julio de este año no obstante

y justo es que me afane en no solo exponer sino motivar el porqué de esta ley sus principales extremos y novedades

en el entramado jurídico institucional y económico público de euskadi

en el momento de su presentación todas ellas de alto interés para las administraciones que formamos parte del consejo vasco de finanzas públicas y que en definitiva

forales y municipales es un hecho que esta ley ocupa un lugar muy concreto dentro de la arquitectura financiera pública interna de euskadi se sabe que tiene que tener un contenido necesario para que se la considere válida se sabe que puede tener un contenido más contingente

el estado de los ingresos presupuestarios anuales de las instituciones comunes y forales y gran parte de los referidos a las instituciones locales vascas también por ello se ha dicho con matices todas las leyes de aportaciones son más o menos iguales nada más lejos de la realidad en mi modesta opinión

algo triste y de mera supervivencia institucional esta ley y con más motivo la que ahora pasaré a describirles aúna todas las características para ser considerada

al complejísimo entramado institucional y financiero vasco la que más obliga al pacto y refuerza la visión más unitaria de la hacienda pública vasca al completo

de atender equilibradamente la necesidad de recursos y la suficiencia de los mismos dentro de un sistema fiscal definido para mí pues no es una ley cualquiera es una ley que representa una parte

heredera directa del estatuto de la ley de territorios históricos y del propio concierto económico

cierta tranquilidad en escenarios económicos convulsos como los que estamos viviendo particularmente

ley de aportaciones allá por el año dos mil siete y manteniéndose como referente con sus principios y prórrogas tanto en la gran recesión

covid dicho esto y yendo ya al concreto proyecto de ley comienzo por reafirmar

expuso en esta misma sede a propósito de la presentación del proyecto de ley de aportaciones anterior

al confesar que creemos que la norma que hoy votamos es un paso positivo

a todas las instituciones afectadas porque es lo más adecuado y equilibrado que se podía plantear en la coyuntura actual es el proyecto de ley

de la gestión del concierto económico es el proyecto de ley más adecuado porque garantiza a todas las instituciones vascas una situación financiera estable y es el más adecuado porque si en los próximos años aparecieran nuevos elementos en el modelo

la segunda idea que quiero resaltar para distinguir esta ley de aportaciones de todas las anteriores es que es la primera vez que se acomete una ley de aportaciones

de los municipios al consejo vasco de finanzas públicas tras la ley de instituciones locales de euskadi aprobada

debo decir que ello ha tenido lugar con toda naturalidad tanto política como institucional

lo decía antes una hacienda pública vasca única

en el país se refiere beraz gaurko

el artículo veintidós de esta misma ley de territorios históricos establece que será el consejo vasco de finanzas públicas

de recursos y la determinación de las aportaciones de cada territorio histórico a los gastos presupuestarios de la comunidad autónoma con vigencia para períodos mínimos

a juicio del consejo que aconsejen su vigencia para uno

espero que por poco tiempo vigente ley de aportaciones o ley dos barra dos mil siete de veintitrés de mayo se aprobó inicialmente para el quinquenio dos mil siete dos mil once pero una vez finalizado el quinquenio se ha venido prorrogando en aplicación de la cláusula de prórroga automática prevista en su disposición final por lo tanto han sido quince años cincodiez de prórroga de una metodología sólida que ha funcionado y ha garantizado la estabilidad de nuestra estructura institucional

dos barra dos mil siete las instituciones públicas vascas han contado en su conjunto con la financiación adecuada para poder desarrollar las competencias que tienen

de la comunidad autónoma de euskadi realizado en el año dos mil dieciocho no cabe duda de que han pasado muchos años sin contar con una nueva metodología de distribución

el pasado quince de julio de dos mil veintiuno se produjo el acuerdo necesario en el seno del consejo vasco de finanzas públicas un acuerdo que ha contado con el aval unánime de todas las instituciones quiero repetirlo con el aval unánime de todas las instituciones

ya es un valor importante en sí mismo los principios que han inspirado la nueva metodología como no podía ser de otra manera son los previstos por los preceptos de la ley de territorios históricos tanto en lo que respecta

como a los principios que rigen la distribución de recursos entre los distintos niveles institucionales banaketaren ezaugarri orokor hauek

estas características generales se refieren especialmente a una parte del modelo el llamado modelo de distribución vertical de los recursos que determina las relaciones financieras entre las instituciones comunes y el conjunto de los órganos forales

completa el reparto interinstitucional de los recursos al determinar cómo debe producirse la contribución de cada territorio

respetando que primero se adopten criterios que estimulen el esfuerzo fiscal segundo se utilicen criterios que desde el principio de suficiencia presupuestaria procuren una política de gasto corriente global medio por habitante

y por último que la aportación de cada diputación foral se determine básicamente en proporción directa a la renta de cada territorio histórico y se pondere en forma inversamente proporcional a la relación entre el esfuerzo fiscal de cada territorio histórico y el esfuerzo fiscal medio en el conjunto de la comunidad autónoma

berrantolatu dira asimismo se han actualizado aquellos aspectos que se derivan de la aplicación de la metodología de señalamiento de cupo o de acuerdos adoptados por la comisión mixta del concierto económico

de financiación que pueda adquirir el estado en ámbitos de competencia de las comunidades autónomas o del régimen específico de financiación de determinados traspasos de servicios y con el objetivo de facilitar la interpretación del texto se han adaptado aquellas cuestiones que el contexto actual la experiencia

y se ha explicitado el procedimiento a seguir en determinadas situaciones no contempladas en la ley actual como es la valoración de traspasos no integrados en el coeficiente vertical desde las instituciones comunes a las diputaciones forales horrenbestez

definitzen dira de los recursos a distribuir se detraen dos conceptos por un lado las deducciones procedentes de la metodología

y por otro la deducción especial por la cantidad correspondiente a la realización por parte del gobierno vasco de las políticas de planificación

económico y las medidas tendentes a asegurar la estabilidad política y económica bigarren kapituluak baliabideen banaketa bertikalaren ereduari heltzen dio el coeficiente vertical se incrementa del setenta coma cuatro por ciento al setenta coma ochenta y uno por ciento como resultado de la integración de la financiación específica correspondiente a los traspasos de funciones y servicios

así como a los recursos que desde las instituciones comunes se trasladan a los territorios históricos en base a una contribución

la cartera de servicios sociales que pasa de veinte a treinta y cinco millónes de euros así como la integración de la cuantía correspondiente a las políticas de fomento del euskera y la planificación la normalización lingüística en la financiación general de los municipios

sobre productos farmacéuticos etcétera incluso el último traspaso de prisiones

el señalado incremento de la partida destinada a financiar la cartera de servicios sociales de veinte a treinta y cinco millónes

es un claro exponente de compromiso de las instituciones vascas para que atendiendo al reto que va a suponer el envejecimiento de la población

un desarrollo pleno de la cartera de servicios sociales el tercer capítulo se destina al modelo de distribución horizontal que mantiene en sus mismos términos

por acuerdo unánime de las instituciones representadas en el consejo vasco de finanzas públicas

la forma en que cada uno de los territorios debe contribuir a la financiación de los recursos atribuibles a las instituciones comunes así como las normas que regirán la distribución interterritorial de las obligaciones y derechos derivados de la metodología de cupo o la distribución de los ajustes internos a la recaudación

y también se mantienen las ponderaciones de los componentes basadas en los criterios de renta y esfuerzo fiscal expresamente señalados en la ley de territorios históricos así se mantiene en el setenta por ciento el peso relativo del pib

y en el treinta por ciento la ponderación de la inversa del esfuerzo fiscal relativo ponderada por la respectiva capacidad recaudatoria de cada territorio

el cuarto capítulo regula el fondo general de ajuste cuyo objetivo sigue siendo asegurar que salvo causas derivadas de diferencias normativas o de gestión el peso relativo de la recaudación de cada diputación foral una vez deducida la contribución al propio fondo alcance el noventa y nueve por ciento

como novedad el límite máximo del fondo general de ajuste pasa del uno por ciento de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas al uno coma cuarenta y cinco por ciento el incremento en la cuantía máxima del fondo general de ajuste aumenta las garantías ya establecidas en el modelo de distribución de recursos para los territorios históricos sobre todo si tenemos en cuenta que como resultado de los ajustes interterritoriales de recaudación

y por el impuesto especial sobre la electricidad más del cuarenta por ciento de la recaudación de gestión propia de las diputaciones forales es objeto de

supone ya un primer paso de reequilibrio otro aspecto novedoso

este pasa a estructurarse en dos tramos diferenciados el primer tramo se instrumenta de igual forma que en el fondo regulado en la ley dos barra dos mil siete de aportaciones tiene como límite el uno por ciento de los recursos a distribuir y al mismo deben contribuir las instituciones comunes y las diputaciones forales

el segundo tramo del fondo general de ajuste se activará cuando por aplicación del primer tramo no se haya alcanzado para todos los territorios la garantía del noventa y nueve por ciento

y a diferencia del primer tramo la contribución de las instituciones comunes se establece en un cincuenta por ciento y el restante cincuenta por ciento deberán

como todos ustedes saben ya conocen el origen de este segundo tramo se encuentra en el acuerdo del consejo vasco de finanzas públicas

del año diecinueve y que tal y como lo anunciamos en su momento podría constituir un primer paso para la nueva metodología de la ley de aportaciones como así lo ha sido

del mismo modo se han seguido las recomendaciones realizadas tanto por la ley de instituciones locales de euskadi como por el análisis general realizado en dos mil dieciocho

artículo veintiuno establece con carácter de recomendación

que los criterios para el citado reparto procuren una política de gasto corriente global y equitativa y solidaria y se fijen atendiendo al menos a la población

organizativa de las entidades locales de cada territorio histórico por su parte el capítulo sexto engloba de forma similar al capítulo cuarto de la ley de aportaciones vigente

de distribución así como las obligaciones de información que se derivan de las mismas que incorpora un nuevo precepto dedicado a la liquidación de la participación municipal finalmente se mantiene la disposición final que prevé la prórroga automática de la ley lo que garantiza la estabilidad económica y financiera de los tres niveles institucionales y se actualiza el contenido de los anexos primero y segundo

y a la identificación de los indicadores económicos idóneos para la evaluación

de cada una de las figuras tributarias que influyen en la determinación de los

sin recalcar que el proyecto de ley que hoy les he presentado integra eficazmente en su seno las legítimas aspiraciones financieras de todas las instituciones vascas

y aplica íntegramente los criterios básicos del reparto de los recursos procedentes del concierto económico en definitiva

de solidez y mayor certidumbre a las cuentas públicas en este momento crucial del escenario económico enfocado a la recuperación económica y a la generación de empleo

contar con esta ley aprobada antes del consejo vasco de finanzas públicas del próximo quince de octubre facilitará que todos los niveles institucionales de euskadi elaboren los presupuestos del veintidós

señorías antes de sumergirme en los detalles de este proyecto de ley permítanme algunas consideraciones la mañana de hoy promete ser una versión del club de la comedia con una sucesión de densos monólogos en un diálogo de sordos que concluirá lógicamente sin acuerdo sin que ni una sola de las partes reconozca razón alguna al resto

también se echa en falta algo de pedagogía social más aún cuando vamos a discutir acerca de algo que afecta a toda la ciudadanía al bolsillo de todos los ciudadanos al destino que se va a dar a sus impuestos a sus aportaciones

la opacidad en este plan es clamorosa lo que obliga a la ciudadanía un acto de fe para creer que aquello que aquí se decida será bueno para ella bueno seguramente más resignación que fe o confianza ya se sabe que el que parte y reparte

entonces el consejero azpiazu dijo que la demora en la aprobación de este proyecto de ley se debía a que las instituciones vascas preferían una buena ley que aprobar una normativa con rapidez pero que pudiera resultar insatisfactoria lo recuerda verdad señor azpiazu

que ahora quieren aprobar deprisa y corriendo y que se ha caracterizado por la insatisfacción que ha generado entre las instituciones implicadas

es sangrante que el gobierno vasco remita a esta cámara un proyecto de ley obviando a la oposición al impedir que hagan enmiendas con lo que mejorar o corregir la iniciativa legislativa una muestra evidente del creciente autoritarismo de un ejecutivo que abusa de sus mayorías

que son las más cercanas a la ciudadanía cada vez más concentración de recursos de todos en sus arcas

de que dichas desigualdades además se conocen y se dejan crecer y es la forma en que los impuestos de todos se gastan en construcción nacional de la ensoñación independentista y me centro en los detalles el coeficiente vertical se incrementa en un cero coma ocho por ciento según nos indican como consecuencia de las nuevas transferencias asumidas por el gobierno vasco

en el modelo de distribución vertical que plantean además incrementar en quince millónes de euros no hay más explicaciones nada concreto sí son muy concretos a la hora de precisar los gastos del gobierno vasco a financiar con ingresos derivados de la gestión del concierto económico diez mil doscientos cuarenta y dos millónes cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y cinco euros

son una estimación es una cantidad que puede variar y que además puede condicionar los porcentajes del coeficiente vertical de dónde salen esas cantidades por qué en el caso del gobierno vasco la precisión es mayor y no en el de las instituciones forales

y ocultarla entre tanto millón de euros exigimos por ello máxima claridad máxima transparencia y total concreción

del coeficiente de distribución vertical abriéndose una vía para realizar cualquier ampliación y modificación de sus aportaciones

demasiadas incógnitas sin resolver en un muy denso proyecto de ley y en este sentido el artículo ocho abre la puerta a que esa incorporación de nuevas competencias del estado se traduzcan en un posible aumento del coeficiente pero además lo hacen sin fijar topes

que en ningún caso superaría ese setenta coma ochenta y uno por ciento que se fija en su proyecto de ley por qué no fijan esta cantidad como tope máximo en este proyecto de ley

aumenta un coeficiente que en el año por ejemplo noventa y siete era del sesenta y seis coma veinticinco muy inferior al setenta coma ochenta y uno que acabo de reseñar

que se están vaciando de funciones y competencias a las diputaciones forales y a los municipios o bien que se les está recortando recursos económicos para prestar los mismos o más servicios en cualquier caso este proyecto de ley refuerza algo que ya venía sucediendo que el gobierno vasco es la institución que más gasta y que cada día

precisamente las administraciones más cercanas al ciudadano y las que ofrecen servicios más tangibles

el ejecutivo se confirma como principal gastador mermando la capacidad económica de diputaciones y ayuntamientos

ese incremento del cero coma ocho por ciento del coeficiente vertical

millónes de euros más al año para el gobierno vasco dinero que se retrae del resto de instituciones y que sale en su totalidad del bolsillo de los ciudadanos vascos

no se aclara tampoco por qué las entidades locales reciben como mínimo el treinta y nueve coma veintitrés por ciento de los recursos disponibles del territorio histórico

se establece la recomendación del consejo vasco de finanzas públicas a los órganos forales de los territorios históricos para que destinen como mínimo el cincuenta y cuatro coma setenta por ciento ahora lo que era una recomendación se ha transformado en una obligación pero además reducido en un quince coma setenta y siete por ciento y no queda clara la razón por qué esta cifra treinta y nueve coma veintitrés por ciento y no otra

el incremento del fondo general de ajustes que pasa del uno por ciento al uno coma cuarenta y cinco por ciento es la evidencia de que los desequilibrios crecen con el paso de los tiempos

es la demostración sin duda de que esos desequilibrios entre provincias existen y son conocidos así como la falta de rigor a la hora de detallar cada una de las cantidades un ejemplo de lo que está sucediendo recientemente el diputado general de bizkaia

incrementaba el fondo de servicios sociales al que antes he aludido hasta los treinta y cinco millónes de euros siendo para su provincia la mitad de estos recursos se corresponde esta decisión con las necesidades reales de toda la población afectada por esta nueva norma

así quizá a una lucha entre poderes que nada tiene que ver con los intereses generales de la ciudadanía

que algunos tributos directos que antes se repartían entre todos los territorios se queden en la hacienda foral que lo recauda es el caso por ejemplo del impuesto que grava la producción

a qué intereses obedece este criterio que han tomado se consolida así un país vasco de dos velocidades un ejecutivo y una provincia en la parte más poderosa y rica y los territorios de gipuzkoa y álava dependientes de un fondo de ajustes que debería avanzar hacia el cero por ciento

pongamos por ejemplo la reciente transferencia de la gestión de prisiones una excusa para este gobierno vasco para incrementar el coeficiente vertical

en sus propias arcas diez años de negociaciones señor azpiazu de discusiones que concluyen en un proyecto de ley que no gusta a ningún grupo de la oposición que no nos ha permitido ni siquiera enmendar obviamente nuestro voto va a ser en contra de este texto que hoy se nos presenta

de un gobierno que vende diálogo y practica imposición por todo lo expuesto desde vox solicitamos la devolución del proyecto al gobierno muchas gracias

señorías señor azpiazu bienvenido le echábamos de menos

pero claro es una ley que nos han presentado con tantísimo retraso que se ha convertido esto un poco en el estándar del gobierno no tres legislaturas de retraso la mayoría de las leyes que vienen aquí ya son con tres legislaturas de retraso

y que luego al final la capacidad de control del parlamento

pues no pueden acudir al parlamento bien la ley que nos ocupa hoy es la relativa al proyecto de ley de metodología de la distribución de recursos

es la conocida como ley de aportaciones es la ley que reparte los recursos que recaudan las diputaciones entre los distintos niveles de gobierno que existen que es el local el nivel foral y el nivel autonómico como se sabe

es que en la propia exposición de motivos de la ley pues aquí se habla de que el coeficiente vertical que se incrementa es decir la cantidad que al final acaba absorbiendo el gobierno vasco pasa

al setenta coma ochenta y uno por cierto invirtiendo la última tendencia que había bajado al setenta coma cuatro ahora sin embargo sube y lo que yo

dónde están los informes económicos qué han justificado eso porque sí aquí se habla de no es que pueden subir los gastos etcétera pero dónde están los informes económicos

que los informes en los que aparentemente se ha basado usted y se ha basado su equipo para justificar este cambio en la metodología o más que en la metodología

pues creo que no está suficientemente justificado nosotros por eso solicitamos la devolución en este caso no tanto al gobierno sino en virtud de lo que establece la ley de territorios históricos a que el consejo vasco de finanzas o que en el seno del consejo vasco de finanzas algunos de cuyos distinguidos miembros por cierto están aquí hoy con nosotros pues pueda reelaborar el presupuesto

es una ley de aportaciones perdón esencialmente un proyecto de ley esencialmente opaco

incurre en unas contradicciones importantes pero en la exposición de motivos se dice el coeficiente vertical se incrementa se incrementa bastante del setenta coma cuatro al setenta coma ochenta y uno pues como consecuencia como resultado de la integración de financiación de traspaso de funciones tal tal

por lo tanto el gobierno tendrá más gasto el gobierno necesita más capacidad en este caso de asumir

porque ha aumentado los recursos que las instituciones comunes o sea el gobierno vasco tiene que trasladar a los territorios históricos en base a una contribución mayor destinada a financiar la cartera de servicios sociales

me lo quedo y luego se lo vuelvo a dar para que financien los servicios sociales cómo es esto

no quitárselo no es que se lo quiero quitar pero luego qué hago lo redistribuyo conforme a una serie de criterios internos eso es lo que yo creo que hay que explicar un poco más

esto es una cosa clara además sus portavoces por cierto en otra cámara el congreso de los diputados lo repiten mucho y es curioso porque aquello que ustedes le recriminan constantemente al gobierno central sea cual sea el gobierno de la nación

es decir lo que están haciendo es centralizar la capacidad de gasto con lo cual están condicionando la propia autonomía tanto de diputaciones

creo que va a ser un argumento repetido la gran pregunta que queda aquí sobrevolando este pleno hoy es pero de dónde salen estos números

se lee en profundidad el informe se lee en profundidad sobre todo la documentación económica que se supone que tiene que sustentar o tiene que apoyar

esta proposición o este proyecto de ley y la verdad es que en el anexo uno del proyecto donde aparecen los únicos números bastante resumidos pues hombre ahí yo no voy a datos suficientes que justifiquen esto yo ahí veo

falto de definición sin mucha justificación la verdad es que es algo que se repite tampoco hay una referencia a un año base específico se habla ahí de unas cantidades en el anexo uno donde se dice los gastos que tenemos son estos y tal pero bueno de qué año

a través del consejo vasco de finanzas que se citará entiendo que hoy también por parte de los grupos de la oposición que tardó un tiempo en hacerlo en dos mil dieciocho

el informe es de dos mil dieciocho que es el informe que se utiliza en parte así se dice como base para la presentación de este proyecto

de dos mil dieciocho que si uno se lo lee ve que utiliza datos de dos mil quince

para presentar este proyecto de ley de aportaciones a mí me sorprende mucho la simplicidad sobre todo porque cuenta usted con un equipo muy bien preparado

la excesiva simplicidad de los números que nos han enviado yo creo que aquí

quiénes son los más afectados quiénes son los perjudicados de este proyecto de ley de aportaciones los principales perjudicados de este proyecto ley de aportaciones van a ser los municipios y las diputaciones forales esencialmente

su financiación estableciendo un límite de financiación mínimo muchísimo más bajo que pasa del cincuenta y cuatro coma siete al treinta y nueve pero el argumento es el mismo es decir se baja

hay una cuestión también que sobrevuela parte de este grandísimo retraso

parece que esta legislatura que cuentan con una mayoría absoluta en este parlamento muy compacta

el fondo general de ajuste también que fue parece ser una medida excepcional que se crea en un momento determinado para establecer una compensación como usted antes ha mencionado también para establecer una compensación como consecuencia de posibles desigualdades que existen entre territorios es normal si es un tema complicado yo no digo que no lo sea pero claro ese fondo general de ajuste pues que era un parche al final se acaba consolidando

mismo sistema que a nivel nacional con los fondos de compensación interterritorial en muchos casos no a lo que voy es que me parece que

pues adolece de mucha claridad y nos traen un proyecto de ley con una fórmula ahí que aparentemente

tampoco están demasiado desarrollados y como hito principal que se aumenta la recaudación o se aumenta en este caso mejor dicho la cantidad que se lleva el gobierno vasco y nos dicen que esto es la ley maravillosa que va a permitir una financiación más justa más social más tal esos son todos los argumentos que oiremos con el presupuesto imagino pero a mí no me convence el reparto este

no parece por tanto que tampoco se hayan seguido mucho todas las recomendaciones de ese informe que se encargó en su momento

otros argumentos que podemos extender también a ellos que es el relativo a la falta de homogeneización de criterios contables que esto

del consejo vasco de finanzas no oiga lo que en un territorio se llama de una manera en otro territorio se llama de otra manera se financia con cargo a otra partida en fin hay unas ciertas diferencias

es complicado establecer muchas veces estos criterios de redistribución territorial que es entiendo lo que pretenderá también el gobierno

esta falta de homogeneización en los criterios contables tiene unos riesgos manifiestos cuál es el riesgo si no llamamos lo mismo

a la hora de establecer analizar cuáles son las necesidades de ingresos de gastos etcétera

hay un riesgo un riesgo muy evidente de que se infravaloren o se sobrevaloren ciertas competencias ciertos gastos y demás por eso en el fondo señor azpiazu todo esto lo que nos parece

a mí personalmente a nuestro grupo en concreto esto nos parece que es simplemente una vuelta de tuerca más

por la vía de la financiación por el aumento de la financiación

una de las constantes del gobierno vasco es la falta de ejecución del presupuesto completo que tiene

está intentando justificar o sobre todo amasar más cantidad de dinero en detrimento de instituciones locales que prestan gran servicio como diré a continuación y luego además el propio presupuesto que ya vienen manejando siempre adolece de falta de ejecución siempre y luego además

porque hemos sido incapaces de ejecutar el presupuesto no es algo positivo más bien todo lo contrario

y lo hemos visto con el covid las instituciones locales no solo las diputaciones que tienen una gran cantidad de atribuciones de tipo social

las propias entidades locales tienen un papel muy importante de cara al ciudadano y de cara a gestionar y sobre todo a reconducir etcétera las demandas que hacen los ciudadanos digamos que el ámbito local es la primera línea o ha sido la primera línea lo es habitualmente pero casi siempre para el ciudadano para el ciudadano de hecho

una única administración en general una única administración donde quien pone la mayoría de las veces la cara y sobre todo la otra mejilla es el ayuntamiento ayuntamiento al que insisto

quitándole o cortándole su vía principal de financiación que es esta por eso yo creo sinceramente que esta ley de aportaciones este proyecto de ley de aportaciones que se nos presenta se podría hacer mucho mejor nosotros somos favorables evidentemente a que se apruebe un proyecto una ley de aportaciones una ley que sea justa

lo que pasa que como siempre hemos dejado todo para el último momento y al final se nos ha acumulado todo se nos acumula tal la reunión del consejo de finanzas luego claro al parlamento tampoco se puede venir a comparecer

hay otro tema importante que con esto ya voy a ir acabando y es que en realidad el aumento coeficiente vertical que lo que hace es aumentar los recursos en manos del gobierno vasco claro se corresponde con el aumento del gasto corriente corresponde con el aumento del gasto corriente los informes del consejo vasco de finanzas y este último en concreto también nos hablaban de la necesidad de que se moderara también el propio gasto corriente o por lo menos se dispusieran análisis etcétera

por lo menos lo que es el gasto habitual lo que es el gasto estructural denominado sabe mucho mejor que yo el gasto corriente cosa que tampoco se hace por eso señor azpiazu

lo que solicitamos es que se devuelva este proyecto de ley para que en el seno del consejo vasco de finanzas se reelaboren síntesis y con esto termino se trata de un proyecto de ley que es oscuro

estos cambios tan importantes en los coeficientes en segundo lugar es un proyecto de ley que va a aumentar considerablemente

del gobierno vasco un gobierno vasco que ya por cierto ha demostrado su falta de capacidad de ejecutar el presupuesto con el que ya cuenta y en tercer lugar y esto yo creo que es muy importante se trata a las entidades locales y aquí están algunos de sus máximos representantes casi como si fueran menores de edad

de la distribución de competencias de responsabilidades entre unos y otros pero aquí prácticamente

casi casi en el tutor legal de las diputaciones y por supuesto de los ayuntamientos por todas estas razones señorías nuestro grupo

egun on señor lehendakari señor azpiazu el estatuto de gernika la ley de

reconocen las peculiaridades y el devenir histórico de nuestro país y son por tanto la cristalización también de una voluntad colectiva social que por definición no puede estar nunca del todo cerrada los acuerdos de esta naturaleza los pactos sociales nacen con voluntad de perdurar

ilimitada hoy discutimos aquí al menos parcialmente su plasmación fiscal y financiera este factor diferencial que tiene nuestro territorio con respecto al territorio de régimen común del estado diferencia que emana de ese devenir histórico y colectivo que dota a este país de capacidad de recaudar y gestionar los recursos propios para luego

la ley de aportaciones que hoy discutimos establece las claves de reparto vertical sobre la recaudación de las diputaciones forales

del gobierno vasco establece asimismo el porcentaje mínimo

es por tanto crucial y aquí está para nosotros y nosotras la clave porque dota entre otras cosas de capacidad financiera a las administraciones públicas con menor capacidad recaudatoria la peculiaridad del régimen del concierto a diferencia de las comunidades autónomas del territorio de régimen común implica que no

financiación del estado eso nos obliga a financiar los gastos de nuestras instituciones con impuestos o emisiones de deuda pública que deben ser aceptadas por los mercados es cierto que nos dota de una capacidad normativa propia de infinitas posibilidades y derivadas pero también es cierto y esto es desde nuestra consideración y así lo hemos expresado más de una vez que no aprovechamos

este marco normativo propio para aplicar una fiscalidad más justa y equitativa su diseño tiende en muchos casos a hacer del gasto público uno excesivamente procíclico lo cual nos impide responder con eficacia a las crisis económicas amortiguando las caídas de la actividad económica con aumentos suficientes del gasto

esta ley bajo consideración de elkarrekin podemos ezker anitza era una oportunidad entre otras cosas para repensar las aportaciones estableciendo mecanismos que atenúen el impacto perjudicial del criterio de riesgo compartido

por tributos concertados para los ayuntamientos del treinta y nueve coma veintitrés por ciento pero solo una vez producidas las deducciones procedentes de la metodología de señalamiento del cupo

la aportación general a las instituciones comunes la valoración de los nuevos traspasos desde las instituciones comunes a las diputaciones forales el importe neto del fondo general de ajuste a la postre los municipios una vez tenidas en cuenta todas las deducciones

concertados en definitiva los municipios vascos adolecen del mismo problema de infrafinanciación que aqueja a los del resto del estado hay otros modelos y así podemos citar el caso de países federales como austria

subnacionales o alemania donde ese porcentaje es del treinta y ocho por ciento según datos de la oce y la escasa financiación municipal impide una

a partir de un conocimiento preciso de las necesidades reales de la ciudadanía teníamos la oportunidad de diseñar de aportaciones que redujera el carácter procíclico de la financiación que reciben los municipios y que hubiesen habilitado a las diputaciones y gobierno vasco a gestionar con niveles de endeudamiento más elevados en ciclos negativos en nuestra opinión se ha perdido una oportunidad histórica para repensar todo el modelo fiscal vasco y de abrir un proceso de reflexión con el estado para hacer posible un modelo de hacienda funcional que reemplace al obsoleto y conservador concepto de hacienda mal llamada

esta oportunidad perdida llega además como lo hace este proyecto de ley de aportaciones una de cada tarde y para ser aprobada además con lo que a todas luces será una mayoría es verdad que suficiente pero que consideramos escasa teniendo en cuenta la enjundia y la importancia de la ley porque a la vista está

que esta ley de aportaciones solo saldrá con el apoyo de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno

a subrayar este hecho el gobierno vasco junto con las diputaciones forales

más de una década después del vencimiento de la vigente un reparto de recursos acordado en el pico de la burbuja inmobiliaria y que se mantuvo vigente

por los aires la ley dos barra dos mil siete ha sido prorrogada de forma irresponsable

en distorsiones que no han tenido en cuenta las circunstancias de reparto territorial de renta en nuestra comunidad autónoma es incomprensible e inexcusable

un bloqueo de diez años hoy una década después el gobierno vasco nos propone una vez más un acto de fe

para el devenir institucional de euskadi ha sido elaborada en un

cerrada un cónclave a puerta cerrada sin testigos sin adversarios políticos en manos básicamente del partido nacionalista vasco aunque por supuesto

creemos que hubiera sido de recibo que el proyecto adjuntase como ya se ha dicho aquí los informes técnicos pertinentes que debieran acompañar el texto normativo y que nos permitieran dilucidar la idoneidad o no de algunos de los preceptos desarrollados en la ley que hoy aquí

tres años pueden parecer pocos pero las transferencias competenciales que han tenido y tendrán lugar en los próximos meses unidos al mayor shock económico de la historia reciente

estimaciones y escenarios que incorporasen estos cambios y los cambios futuros por ejemplo

con el estado por tanto en los próximos minutos

como en lo relativo a su contenido al menos en lo que a su contenido público y

sobre las discusiones que hayan podido darse a puerta cerrada entre los líderes territoriales del pnv no nos podemos pronunciar en primer lugar nos vemos

de que la definición de los criterios de reparto en sendos cónclaves a puerta cerrada

son una forma en nuestra opinión de hurtar a la participación de los grupos parlamentarios en este caso

pero en cualquier caso nos parece que es poco transparente y poco democrático en este sentido

no parece justificable que el coeficiente vertical se anuncie a la ciudadanía en un proceso que recuerda a la elección del papa de roma en un cónclave cargadísimo tras un proceso inescrutable y hermético este coeficiente

al setenta coma ochenta y uno por ciento justificado fundamentalmente y es básicamente la única referencia que se da en el texto

años esto no deja de sorprender puesto que los cambios sustanciales en el nivel de competencias que asumió el gobierno vasco

el reparto competencial entre las distintas instituciones vascas si de alguna manera lo justifican en las nuevas competencias entonces cabe concluir que el cupo

únicamente se tiene en cuenta la participación del pib de cada territorio

del país vasco con un pequeño ajuste para tener en cuenta el esfuerzo fiscal que realiza cada territorio este ajuste pondera tan solo un treinta por ciento en el cálculo del coeficiente cabe preguntarse si el esfuerzo fiscal no debería tenerse más en cuenta

una mayor ponderación por otra parte este criterio aunque aparentemente justo ignora otros indicadores que pueden tenerse en cuenta para reflejar

tales como las asimetrías en la afección de las crisis económicas las servidumbres que puedan originar determinadas infraestructuras o los desequilibrios comarcales

no parece que las ausencias en relación a estas consideraciones perdón las ausencias en relación a estas consideraciones en nuestra opinión son clamorosas

parece haber ignorado algunos de los enormes retos contemporáneos a los que nos enfrentamos como la necesidad de responder al cambio climático la brecha salarial de género las fragilidades que ha puesto al descubierto la pandemia de la covid la recuperación económica

que creemos deberían haberse valorado a la hora de calcular los coeficientes verticales y horizontales y por terminar con las grandes ausencias tampoco recoge su proyecto de ley algo tan fundamental como escenarios en el que las nuevas figuras tributarias

de un solo uso o el impuesto sobre determinados servicios digitales puedan acabar influyendo en las arcas y en el nivel de recaudación en fin creemos que estos tres

invalidan en buena parte los preceptos de este texto normativo

es más bien un reciclado un corta pega del anterior con ciertos ajustes en cuanto a los coeficientes y porcentajes por otro lado cabe

suele ocurrir es aparentemente muy técnico pero tremendamente ideológico en el fondo a pesar de que se les llena la boca hablando de gasto expansivo de reconstruir la economía desde lo público del fin de la austeridad lo cierto es que no se han alejado en el fondo

de la pasada década en el texto se presenta como virtuoso y además utiliza este término moderar el crecimiento del gasto corriente una y otra vez creemos que debiéramos de abandonar ya esas premisas

el crecimiento del gasto corriente no debe ser moderado

y a la gestión del ciclo económico el gasto público cuando responde

de expansión de la función pública para el estímulo y de liderazgo del desarrollo económico siempre repercute positivamente sobre el conjunto de la sociedad y sobre la propia hacienda pública

una década desastrosa la pasada en lo económico perniciosa en lo social y que ni siquiera ha cumplido sus objetivos en términos de deuda pública

aprendido gran cosa paso

el límite máximo del fondo aumenta hasta el uno coma cuarenta y cinco por ciento y como

el modelo de reparto de este porcentaje pero la verdad es que la pregunta que nuestro grupo parlamentario se hace es qué criterios determinan nuevamente porque los desconocemos

el dos por ciento el tres por ciento o el cero por ciento no creemos que haya detrás aparente además creemos que perpetúa el desequilibrio presupuestario existente

fin lo que refleja el fondo general de ajuste es un fallo en el sistema de la ley de aportaciones creemos que

a las necesidades territoriales existentes y por último se establece un porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados del treinta y nueve coma veintitrés por ciento

a ser un coeficiente determinado legalmente pero no hay ningún informe nuevamente

es el adecuado en función del reparto competencial al igual que en el caso del coeficiente vertical consideramos que ese porcentaje debe determinarse dentro de un proceso presupuestario debatirse con transparencia y votarse en su caso donde corresponda sigue aplicándose el criterio de riesgo compartido que nos parece lesivo fundamentalmente para los ayuntamientos y contradictorio con el principio de suficiencia financiera

endémica en euskadi y así se demostró a raíz de la pandemia lo es desde luego en todo el estado

en esta propuesta de ley de aportaciones la covid diecinueve ha puesto de manifiesto la importancia crucial de lo público pero también

encima de la mesa hemos entendido asumido la importancia del papel de lo local cuando se producen crisis de estas dimensiones nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos ezker anitza

fundamental una revisión en profundidad del sistema de financiación municipal y esta ley era una oportunidad para poder abrir ese melón

y también creemos que no se les ha tenido en cuenta más allá de su presencia es verdad

tampoco ha habido acuerdo en relación con esta propuesta en el marco de eudel y tampoco se ha hecho caso

por ejemplo una y además figura en alguna de las creo recordar alegaciones

una recomendación muy concreta que era que se incluyera un criterio o criterios homogéneos de distribución a través de la ley de aportaciones que permitirían después a las diputaciones forales

criterios de reparto entre los municipios creemos que eso bueno pues ha sido también un error de cálculo no haber tenido más presente

los municipios más allá de tener presencia en el marco del consejo vasco de finanzas públicas

que realmente no es el que va a ser porque no va a ser de un treinta y nueve por ciento sino que realmente va a ser bastante bastante menor después de la aplicación de las deducciones creemos

con los informes y estudios preceptivos tanto en este caso como en el del coeficiente vertical por tanto y por terminar

alegaciones así como por lo opaco del proceso por la falta de informes justificativos que acrediten cuáles son las razones de los cambios que se establecen en la nueva ley de aportaciones por el hecho interesado y en fin manifiestamente en nuestra opinión cínico que se hayan esperado diez años a disponer de una mayoría

con otras fuerzas parlamentarias en el debate y la fijación de los criterios de esta ley creemos que por todo ello y además también por el escaso

el pagafantas del sistema de financiación público vasco creemos que por todo ello no hay razones desde luego

esta ley de aportaciones eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

lehendakari consejero egun on guztioi los socialistas vascos

ya que va a aportar estabilidad financiera y presupuestaria

elaboren los presupuestos del ejercicio dos mil veintidós aplicando la nueva metodología una metodología que recoge las reivindicaciones de las distintas instituciones han venido reclamando y sobre todo pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la ley de las instituciones locales de euskadi

donde entre otros aspectos se establece por ley un porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados

los grupos de la oposición han criticado aspectos de forma y de fondo sin embargo hay que destacar que se ha trabajado y alcanzado un acuerdo por

donde están representadas todas las instituciones inclusive eudel y no ha habido ninguna iniciativa o pregunta de control al gobierno por parte de estos grupos para conocer el alcance de los trabajos en torno a esta materia

el consejero de economía y hacienda ha explicado detalladamente los cambios en los aspectos más significativos de la ley y no quiero repetirme pero sí me parece importante destacar que la actualización del coeficiente vertical al incorporar los nuevos traspasos asumidos por el gobierno vasco en los últimos años

mayor financiación del gobierno ya que lo que hace es incorporar dichas competencias que antes se contemplaban fuera al propio coeficiente y en cualquier caso tampoco sería un problema poder contar con más financiación de cara a los presupuestos no les parece

el gobierno vasco ha incrementado en diez coma cinco millónes el fondo social

y no solo incrementa este fondo social fundamental en la gestión de los servicios sociales por parte de los territorios históricos sino que se mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada diputación foral

y por tanto se siga buscando el equilibrio territorial

pero lo cierto es que esta ley no necesitaba romper con el modelo anterior sino actualizar y recoger los aspectos acordados ya que una

y suficiencia financiera para acometer los proyectos y programas de gobierno así como sus competencias por tanto

es importante destacar el acuerdo en torno a una herramienta financiera tan importante como la ley de aportaciones fundamental dentro de nuestro sistema financiero y fiscal para poder elaborar los presupuestos de las distintas instituciones

en el seno del órgano donde están representadas todas ellas por tanto hoy es un día para alegrarnos de aprobar una ley que emana de un acuerdo por unanimidad que representa un instrumento de estabilidad que incorpora las reivindicaciones realizadas por las distintas instituciones a lo largo de los años y que ratifica

de la metodología empleada nada más muchas gracias eskerrik asko

para el funcionamiento de las instituciones de nuestro país una ley que fija las bases sobre la que los ayuntamientos las diputaciones y el gobierno vasco deben desarrollar las políticas

semanalmente de inversión social de desarrollo económico y de un país con futuro pero todo ello depende en gran medida de la ley que hoy debatimos

diez largos años anunciando acuerdos inminentes en cada reunión del consejo vasco de finanzas de final de año

en el que algunas diputaciones han mostrado su descontento en reiteradas ocasiones con el reparto de los recursos y bajo gobiernos de diferentes colores incluso del partido nacionalista vasco diez años que cuando una

el proyecto de ley que tenemos hoy encima de la mesa parece una broma de mal gusto porque señorías para este viaje

inolako irtenbiderik ematen lege honekin si antes se creó el fondo general de ajuste

un fondo extraordinario para corregir posibles desequilibrios en el reparto de los recursos económicos

respecto a la ley del dos mil siete lo único que hace es consolidar esos fondos es decir esta ley asume que seguirán los desequilibrios porque no se ha hecho ningún cambio sustancial para eliminarlos del tablero de juego

modu bat bien como ya se ha dicho el procedimiento legal de aprobación o de tramitación de esta ley pues no ayuda mucho

pero realmente la falta de información y la opacidad de este gobierno que ni siquiera ha llamado para aunque sea no sé explicar

de las bondades de esta ley pues la verdad que hace todavía más difícil que se hagan esos acuerdos lege hau

se fija como se ha dicho ya un porcentaje mínimo que destinará a los órganos forales a las entidades locales en concepto de participación en la recaudación de los tributos concertados pero

que esa cantidad sea suficiente para que los ayuntamientos de nuestro país presten los servicios

gure bozka aldekoa izango da en este debate se han nombrado ya las principales características de este proyecto de ley

pero las voy a resumir porque me parecen muy interesantes y muy muy importantes y en resumen uno

y segundo las modificaciones que incorpora el proyecto responden a circunstancias objetivas en primer lugar

y recaudatoria que son las diputaciones la asunción de nuevas transferencias en el periodo de vigencia de la norma actual que son quince años porque en los últimos diez ha estado prorrogado

vertical esto es el porcentaje de la recaudación total destinado al gobierno vasco que pasa a ser del setenta coma ochenta y uno y en segundo lugar

conservando los coeficientes de aportación actuales pero incrementando el fondo general de ajuste que propicia la compensación interterritorial y que aumenta del uno

las entidades locales que se aseguran disponer de un mínimo del treinta y nueve coma veintitrés por ciento de los tributos concertados que le atañen

su disponibilidad de fondos así los tres niveles de administración vasca ven contemplada la adaptación de la metodología de financiación

de mantener la corresponsabilidad pero también la sostenibilidad del modelo vasco así el próximo

en el reparto de obligaciones pero es más yo creo que esta ley está también más allá de nuestras viejas costumbres no es decir en el acuerdo interinstitucional en este caso gobierno vasco las tres diputaciones

y contenido está el riesgo compartido es decir que las instituciones vascas son solidarias en el caso de no recaudar lo suficiente para desarrollar sus capacidades y competencias y ese es nuestro modelo

para euskadi con diálogo entendimiento y acuerdo entre los tres niveles institucionales de euskadi diputaciones y ayuntamientos ayuntamientos sí y lo recalco porque algunos portavoces se olvidan de su participación en este proceso a través de eudel

la representante de eh bildu indica que eudel no ha tenido información y que se le ha denegado el acceso a la misma

su afirmación cuando eudel en su nota de prensa de quince de julio tras aprobar este acuerdo de su ejecutiva se aprobó califica el acuerdo como el hito más importante después de la lile

usted cree que eudel ha aprobado este acuerdo sin tener documentación alguna y que además sin mirar ningún papel

cómo puede ser que eudel no tenga información cuando fue la que cerró el mínimo municipal o cuando eudel ha sido parte de los grupos de trabajo de la reforma desde la aprobación del informe en dos mil dieciocho

podrían ustedes quizá contrastar con

para que conozcan qué pidieron y qué no y en ver en qué grupo de trabajo estuvieron y en cuáles no pero lo que sí sé porque lo que es constatable

dispuso de la información que consideraba adecuada para aprobar este acuerdo otra cosa es que a ustedes no les guste el resultado pero la realidad es esta y como no les gusta el resultado pues igual lo único que hizo la oposición

porque llamativo es también que indiquen ustedes que no han dispuesto de información suficiente para verificar los cálculos que incorpora este proyecto de ley cuando no han efectuado ninguna pregunta ni solicitud de información y documentación al gobierno vasco nin gu na ezer ere ez

porque con un mínimo interés hubieran preguntado como mínimo como lo han hecho sus compañeros sus grupos políticos en juntas generales en las tres quienes han recibido

el detalle de todos los cálculos aquí en cambio no se ha solicitado información pero eso sí se plantan aquí

cuando ya se ha ofrecido todo tipo de detalle yo con la información disponible he podido resolver las preguntas que planteaban los grupos en sus alegaciones de esta ley

este proyecto de ley por tanto transparencia y claridad

clara demagogia es evidente la bondad del acuerdo

el sailburu y nuestro grupo lo ratifica así que me centraré en responder a las cuestiones formuladas por los grupos en sus alegaciones a ver si con ello replantean su posición aunque sailburu le anticipo que lo veo difícil consenso

y así lo dicen varios grupos no les parece amplio consenso que sea un acuerdo interinstitucional gobierno vasco tres diputaciones y los ayuntamientos a través de eudel aprobado por unanimidad un acuerdo aprobado por los representantes de las instituciones elegidos por la ciudadanía y por tanto

que no están ustedes en la foto porque por ejemplo eh bildu en la decisión sí que está por ejemplo a través de eudel sobre el procedimiento

el que ha comentado que todas estas negociaciones hay que hacerlas en el parlamento como en sede parlamentaria

en qué sede parlamentaria porque tenga en cuenta que tenemos tres niveles institucionales está el parlamento las juntas generales y las entidades locales

con su propia representación por tanto cómo inserta el debate en todas las sedes parlamentarias incluidas las corporaciones y sesiones plenarias cómo sobre todo si entre sus objetivos estuviera el de alcanzar

pero es que además que sea el consejo vasco de finanzas quien apruebe esta modificación de la ley tampoco es ningún capricho esta metodología lo recoge la ley de territorios históricos que fue aprobada en este parlamento con toda la legitimidad democrática

en el consejo vasco de finanzas por unanimidad el gobierno vasco las tres diputaciones y los ayuntamientos y este mecanismo de aprobación está regulado en la ley de territorios históricos

designados por la ciudadanía asumo que en la réplica cambiarán de opinión ya que me parece muy grave acusar de falta de legitimidad democrática

pero la falta de legitimidad no me parece lo más correcto

para dotar de más recursos a los ayuntamientos y a las diputaciones dos consideraciones al respecto primero

y con menos recursos cómo se puede financiar la sanidad la educación la seguridad es decir los servicios públicos principales de nuestra comunidad autónoma cómo luego vendrán dentro de un mes solicitando al gobierno más recursos para el presupuesto de dos mil veintidós porque será según ustedes austero están solicitando reducir la aportación al gobierno vasco y en un mes pedirán más presupuesto

la comunidad autónoma que más ejecuta llamativo también que ustedes siendo miembros del parlamento vasco pidan que el gobierno vasco tenga menos recursos o sea yo no sé cómo digerir todo esto

segunda consideración respecto a la reducción del coeficiente vertical en beneficio de los ayuntamientos y diputaciones

y por el contrario más los ayuntamientos y diputaciones forales sobre la base de qué

y su conclusión es clara y leo literalmente la capacidad financiera de cada una de las instituciones locales de la cae es muy diversa a nivel individual si bien estas en su conjunto

así mismo los distintos niveles institucionales de la cae

estando la distribución del gasto en general reflejada de manera correcta por tanto sobre la base de qué consideran que están infrafinanciados los ayuntamientos

a este intenso trabajo del grupo de expertos al denominado informe lile que por lo que veo en sus alegaciones ustedes también

dos años más o menos la situación de las instituciones concluye que su financiación es adecuada

con ciertas constataciones voy a dar dos se constata que el gobierno vasco tiene unas necesidades de financiación de casi estamos hablando de cifras de dos mil quince

de los gastos que no se derivan de su endeudamiento y las diputaciones del tres en tanto que las entidades locales tienen una capacidad de financiación conjunta del seis coma seis por ciento o sea que primera constatación hay un déficit en cuanto a la financiación por parte del gobierno vasco y las diputaciones pero hay una capacidad de financiación por parte de las entidades locales de un seis coma seis por ciento

financian el noventa y dos coma cinco por ciento de los gastos del gobierno vasco

que no se derivan del endeudamiento porcentaje que se cifra en un ochenta y seis coma uno en las diputaciones y en un cuarenta y nueve coma cinco en las entidades locales

que son sometidos a la ley de aportaciones la autonomía o la capacidad de financiación que tiene cada institución en lo que se refiere al gobierno vasco lo que tiene

que sin eso vamos a decir el gobierno vasco no podría vivir las diputaciones viven de esto en un ochenta y seis coma dos pero las entidades locales en un cuarenta y nueve coma cinco

lo que hace que este grupo de expertos también constate un recorrido fiscal en el ámbito del nivel local

su recaudación y son constataciones del informe lile del informe del grupo de expertos y ahora

indican varios grupos creo que elkarrekin podemos y eh bildu que debería cambiarse su cálculo modificando no solo el porcentaje sino también los parámetros que lo componen

partiendo de lo que establece el informe lile en cuanto a que la financiación es adecuada

creo que debemos ser conscientes además del contexto general y del legal la ley de territorios históricos establece por ley

y tiene que estar basado en renta que es básicamente el pib y la inversa del esfuerzo fiscal que es la capacidad recaudatoria

muchos de los indicadores que señala el grupo elkarrekin podemos que también hoy el señor soto

marca los criterios y por poner un ejemplo que cita podemos no el de la despoblación

y a la riqueza del territorio no si una comarca por ejemplo entra en crisis eso afecta a su consumo a sus excedentes netos a su recaudación final y en definitiva a su producto interior bruto y eso en consecuencia afecta al coeficiente horizontal por tanto señor soto

podemos ya están incluidos en el cálculo del pib eso respecto de la base del coeficiente horizontal

yo les pregunto por qué más y no menos

porque además qué diputación qué territorio aceptaría perder

y porque no solucionaría los desequilibrios más importantes con un simple cambio de porcentaje

también a elkarrekin podemos la primera sobre que ustedes según ustedes se han ignorado

pues precisamente la mayoría de los retos que señalan ustedes son retos que corresponde a afrontar

en su ámbito más específico de competencia por lo tanto cada uno deberá afrontarlos con sus recursos o en su caso y si se viera necesario con acuerdos interinstitucionales concretos que contarán con una financiación específica que ya están previstos en la normativa

y segunda cuestión recrimina la no valoración de los fondos europeos en el coeficiente vertical pero si no afectan o sea no afectan al coeficiente la recepción de fondos

de acuerdo con las competencias que ostente cada una es decir si llega por ejemplo

personas mayores se asignará el importe al nivel competencial correspondiente en este caso en el ejemplo a las diputaciones o sea el vertical es para la o sea este coeficiente es para la distribución de fondos ordinarios entonces aclarémonos porque

con estos argumentos por tanto como pueden observar este acuerdo pretende dar la mejor solución para todas las partes un acuerdo unánime con el fin de distribuir los recursos para poder hacer frente de la manera más eficiente a las políticas de cada institución

y ello aunque se califique de una ley parche porque sustancialmente no cambia nada

el acuerdo es continuista prueba de lo difícil que resulta hacer grandes cambios en un asunto tan delicado más cuando el informe de expertos

curiosamente la presencia de las mismas siglas en diferentes instituciones no habría servido para limar

pero ahora el fin del periodo más agudo de la pandemia el inicio de la recuperación tras el mayor batacazo económico

han propiciado un acuerdo a la vista está que dado el tiempo transcurrido no ha sido sencillo

significa que todas las partes están satisfechas se trata de un tema complejo y por ello ha sido tan larga la gestación del acuerdo no obstante la ley

la financiación específica y la condicionada por ejemplo el impacto del euskera pero todo ello

es por ello que me extraña señor gordillo que usted indique que el aumento del coeficiente vertical es para darle más recursos al gobierno vasco cuando lo que ha alterado el coeficiente vertical ha sido la incorporación al mismo

y la condicionada pero eso no significa que no que le estemos dando más recursos al gobierno vasco lo que debería decir aquí es que los cambios han sido neutrales que se han incorporado las recomendaciones del informe lile y que quien sí ha aportado

aun no exigiéndose por el grupo de expertos o sea vamos a decir saltándose ese informe de expertos

quien ha aportado diez millónes de los adicionales para reforzar las políticas sociales y por qué porque se considera un reto y por tanto una apuesta a futuro que se debe atender y también el gobierno vasco quien aporta en un cincuenta por ciento al fondo de ajuste en ese cero coma cuarenta y cinco adicional que le matizo señora pinedo sí

desde el dos mil diecinueve ya que se entendió que era un paso muy importante para una futura ley también dicho por el consejero azpiazu

siempre que haya un acuerdo interinstitucional y que durante su vigencia pueda ir adaptándose y eso

y en esta línea en su exposición sobre la no neutralidad de los cambios que contempla esta ley el grupo popular solicita moderar el incremento del gasto corriente pero yo señor gordillo le voy a ofrecer unos datos las últimas aportaciones fueron de

justo justo por encima de las aportaciones del dieciocho muy por debajo de las del diecinueve

con lo que señor gordillo el incremento del gasto del presupuesto del gobierno vasco va más bien contra deuda o sea en el año dos mil quince se estaba en una situación

en el veintiuno consecuencia de la pandemia se ha hecho un esfuerzo muy importante para combatir la pandemia

y no fueron precisamente contra aportaciones que se redujeron respecto al dos mil veinte sino contra deuda

si quiere realizar un análisis tan simplista en cada ejercicio porque así

por todo lo que dicen sus alegaciones está claro que no entiende cómo se produce la financiación de las nuevas competencias cuando sea una nueva transparencia

para que aquella que debe ejecutar la competencia bien sea el gobierno vasco o bien sea la diputación y que ahora lo único que se ha hecho ha sido quitar las de financiación específica para incorporarlas al vertical o sea de manera neutral

tres cuatro comentarios sobre defectos en la ley que supuestamente han detectado los grupos y han llevado o llevarán a votar en contra de esta ley

elkarrekin podemos sobre la no incorporación de los nuevos impuestos en la ley simplemente indicarles que si se hubiese celebrada la comisión mixta de concierto económico se hubiesen concertado y estaríamos hablando de esos impuestos incorporados en la nueva ley pero como esa reunión no se había celebrado pues no se pudieron incorporar en la ley los impuestos

pero es que además por ejemplo el impuesto de envases de plástico y depósitos de residuos que usted cita en sus alegaciones ni siquiera está aprobado en la ley o sea la ley que los crea no está pero es que no digo ya concertados es que la propia ley

lo que no tienes competencia ahora con la concertación de los impuestos y el comienzo de la recaudación de los mismos evidentemente se podrán incorporar como tributos concertados al sistema y se ajustarán o no

en su día con los impuestos al valor de la producción de la energía eléctrica

que no están en la ley pero eso no ha impedido que se incorporarán a la recaudación de los tributos concertados y de hecho se acordó su ajuste

no se preocupe que cuando vengan se incorporarán con los mecanismos de ajuste que correspondan

eh bildu y también el grupo popular ciudadanos la ley no ha incorporado

el grupo de trabajo pidió para facilitar el análisis para nada más pero es que además la ley de aportaciones no es el lugar para incorporar criterios contables en su caso si se aprobarán deberían ir por ejemplo en las normas presupuestarias concretas pero no en esta ley

así que eso de que udalei galdetu gabe no es lo más ajustado o sea obviamente no se ha organizado una asamblea de municipios vascos que entiendo que es lo que usted pretende

pero claro está esa apertura del proceso sabemos que muchas veces dificulta el propio consenso porque los debates salen afuera los medios y en algunos momentos el trabajo interno y callado

mi opinión no hace sino dificultar llevar a buen término el proceso

de este consejo vasco de finanzas que veo que ha sido la de trabajar y mucho pero con discreción porque su objetivo era el de llegar a un acuerdo y a un buen acuerdo para todos

dice expresamente página ciento veintiséis se recomienda incorporar la cuantía aportada al fondo extraordinario por tanto se han seguido las recomendaciones lile claramente otra cosa es que hagamos nuestra propia versión del informe

y que lo tomemos como válido para analizar si se han incorporado las recomendaciones a la ley pero se les olvida

cuentan con la financiación adecuada y asimismo los distintos niveles atienden de manera adecuada a las competencias propias de cada uno de ellos básicamente viene a decir que todos estamos bien

bakoitzak bere programak garatu ahal diren hoberen eta efiziente visto todo lo anterior y resumo

que los cambios en las aportaciones son neutrales que el gobierno vasco hace un esfuerzo en políticas sociales con dotaciones adicionales

con estos mimbres no veo que existan motivos de peso por parte de los demás grupos políticos para mantener esta posición tan contraria a un acuerdo interinstitucional tan exitoso

pienso yo y creo que esas

tienen poca solidez y me remito a mis argumentos beste barik

intervenciones y vuestras aportaciones a este debate especialmente quiero

mantenerse en las posiciones que inicialmente se habían manifestado

y los grupos en este sentido han podido contar con dos meses y medio

desde luego hacían falta mayores aclaraciones en otros ámbitos como en las juntas generales

en mandar toda la información porque además es una información

que en ese sentido los parlamentarios la tienen que conocer claro acuerdo unánime por una parte más entre las instituciones que son las responsables de financiar adecuadamente sus competencias y las que

si me permiten tienen en defender sus competencias y su financiación y luego hay un voto unánime en contra de toda la oposición

entender más allá de una pose política de oposición pero una pose si me permiten decirles bastante poco

también también sobre todo además cuando ya se les han dado algunas aclaraciones que yo creo que muchas de ellas han sido contundentes yo voy a intentar aclarar algunas cuestiones más también y en esta segunda intervención intentaré dar una respuesta global a las alegaciones

la exposición de sus puntos de vista siempre respetables desde luego pero sobre los que a continuación comentaré tengo mi propia opinión

seguramente no satisface plenamente a ninguno de los niveles institucionales y todos dejamos posiciones en los rincones

que es la mejor de las normas posibles y de ahí la unanimidad con la participación también de eudel como lo he dicho porque aquí da la sensación por algunas intervenciones que

y es partícipe y ha votado unánimemente con las demás instituciones este proyecto de ley

por escrito su posición en este proyecto pues evidentemente está en las antípodas y ahí no voy a intentar buscar ningún acercamiento porque seguramente usted no quiere y mi acercamiento sería incluso mal considerado

su intervención usted las ha expuesto aquí hoy de una manera profusa y extensa y con la claridad debida también ha hablado de más cosas lógicamente y agradezco su intervención pero sinceramente

ninguna de las opiniones que usted vierte en las mismas y creo también sinceramente que entre algunos errores

que no vienen al caso a propósito de la aprobación de una ley de aportaciones los árboles del denominado informe lile señor gordillo a cuyas conclusiones principales no alude en sus alegaciones no lo han dejado de ver el bosque que

que hoy van a votar para empezar ni es verdad que el incremento del coeficiente vertical detrae recursos con destino a las diputaciones

del gobierno vasco también la señora berrojalbiz ha hecho hincapié en esa cuestión bien al contrario

y si es caso más beneficiosa para las entidades

convierte en incondicionales recursos hoy finalistas incluso los aumenta es decir a igualdad de competencias más financiación incondicionada local

en función de las competencias que el modelo de aportaciones debe contemplar la importancia

también entendemos que es errónea la ley de aportaciones está para establecer un método en el cálculo de la financiación

en forma de aportaciones y no para establecer directrices de las políticas de gasto cuestión que cada nivel institucional

por cierto no le parece sesgado afirmar como hace en sus alegaciones segunda y décima que si algo ha puesto de manifiesto la crisis de la covid diecinueve es la importancia de las políticas asistenciales en gran parte gestionadas por las diputaciones forales y entidades locales yo creo que ha sido importante también pero lo que no puede es olvidarse de la verdadera transcendencia que han tenido las políticas de salud pública y sanitarias

a mí desde luego sí me lo parece tildar de opaco o falto de definición y carente de justificación

porque no hay un listado de competencias de los tres niveles institucionales y una asignación de recursos a cada uno de ellos

contable entre la manera de contabilizar los gastos por parte de las diputaciones forales y las entidades locales no por el gobierno vasco

ciertamente descorazonador prejuicioso y desenfocado mire lo he dicho en mi primera intervención la ley de aportaciones que hoy tratamos

sino para apreciar desde la última ley aprobada las variaciones habidas así como el impacto

que dote de una suficiencia financiera duradera a todos los niveles institucionales y creo que ello se hace con este proyecto coincido con usted

traído antes a este parlamento y que se sigue manteniendo el fondo general de ajuste como método para compensar posibles desajustes

pero la realidad es que ni las prórrogas de la ley anterior han provocado distorsiones en los presupuestos de las administraciones vascas ni se ha encontrado un método mejor para ajustar el cálculo de los coeficientes horizontales extremo este último ya

y que hoy la ley no hace más que ratificar para terminar señor gordillo

solo quiero recordarle que dicho informe constata que hay una mayor dependencia de los ingresos sujetos a reparto

en consonancia con el diferente peso relativo de los ingresos en cada nivel institucional ingresos propios ingresos finalistas o derivados del endeudamiento así constata que mientras los ingresos sujetos a reparto para el conjunto de entidades locales representan el cuarenta y cinco coma siete por ciento del total de los ingresos

de media en las diputaciones forales y hasta el ochenta y cuatro coma cinco por ciento en el caso del gobierno vasco y no creo que desde el año dos mil quince hasta aquí hayan variado

berrojalbiz en definitiva como creo que este proyecto de ley mantiene un perfecto equilibrio de financiación de los tres niveles institucionales y siendo como es producto de un amplio consenso interinstitucional no me queda más remedio con toda humildad señor gordillo que solicitar el voto favorable de su grupo

que su grupo votara en contra de un proyecto que es muy positivo para el conjunto de los ciudadanos que es muy positivo para el funcionamiento normal de las instituciones

de garantizar esos fondos y sus competencias lo han aprobado por unanimidad y que ustedes yo creo que en parte también por desinformación si me lo permite se van a oponer yo diría que

legítimo pero ese es el hecho en tercer lugar el grupo parlamentario de elkarrekin podemos

hoy aquí el señor soto ha utilizado una serie de argumentaciones que oscilan entre lo que considero

con cariño cierto desconocimiento del modelo de financiación interinstitucional interna de euskadi

con el paradigma económico neoclásico que considero respetables pero que por lo que toca al tema de hoy creo que resultan bastante extravagantes

la afirmación de que el riesgo compartido es una invención no se sostiene dado que precisamente el principio de

entre las instituciones vascas de los recursos derivados de la gestión de los tributos concertados sino también

para con el estado nada por tanto que se parezca a la creación de ninguna figura peculiar luego volveré sobre este tema al hablar de la suficiencia financiera

últimas normas aprobadas precisamente en este parlamento por lo que difícilmente

puede argumentarse que dicho procedimiento o que el consejo vasco de finanzas órgano creado por la propia ley de territorios históricos carecen de legitimidad

o que funcionan de manera oscurantista en resumen este proyecto de ley

es la ratificación de un acuerdo entre ejecutivos tal y como así lo han querido las normas de las que emana la propia ley de aportaciones

ni siquiera el procedimiento de votación no entender que la ley que hoy traemos aquí se mueve en terrenos ya fijados por otras normas y querer a su través modificar

juicio de valor parece también tratar de decir que existe una falta de rigor en los cálculos

sobre la valoración de competencias esta no es la primera ley de aportaciones lo que tal vez pudiera justificar dichas exigencias sino que es la décima

por lo que se han tomado en consideración con aporte documental precisamente aquellos elementos objetivos que permiten comprobar las variaciones en el reparto competencial entre la última ley de aportaciones y esta a lo que se ha unido además la aportación de las conclusiones del análisis general de competencias

además como le decía al principio tampoco han solicitado información este consejero está disponible para hablar con cualquier grupo en cualquier momento y enviar cualquier información o dar cualquier aclaración si hasta ahora no se ha tenido en cuenta yo creo que esto lo podemos tener en cuenta también de cara al futuro dicho informe además

lejos de ignorar que los ayuntamientos carecen de capacidad normativa en materia fiscal lo que resulta falso también concluye que los municipios tienen un recorrido fiscal superior al del resto de instituciones vascas al no depender

como así les ocurre a las instituciones comunes y a los órganos forales

siendo la parte más doctrinaria de sus obligaciones identificar el paradigma económico neoclásico sustentado en el principio de estabilidad presupuestaria

arbitrarias que no tengan relación con el bienestar de la ciudadanía es ciertamente una opción política pero hoy hoy señor soto no estamos hablando de modelos económicos porque no toca el esquema que usted propone en lo que es un modelo económico concreto resulta hoy alejado de la realidad

hace que las aportaciones como cualquier otra ley deban moverse en el entorno económico de la unión europea y en este caso precisamente no estamos hablando de en qué gastar brecha salarial cambio climático etcétera como usted dice

de los tributos concertados en función de las competencias de cada nivel institucional

al hablar de presupuestos no debe confundirse esta ley de aportaciones con las políticas de gasto es decir con la ley de presupuestos ni con la política tributaria aplicable a la comunidad autónoma de euskadi que se instrumentan mediante normas fiscales correspondientes

intenta dar satisfacción al equilibrio interinstitucional en materia de suficiencia financiera y en este sentido el principio de riesgo compartido no contradice dicha suficiencia financiera y menos la de los municipios ya que ninguna ley posterior al informe lile en lo que corresponde a las instituciones comunes ha supuesto carga financiera para los municipios antes bien la conclusión final del informe lile establece que las instituciones locales de euskadi en su conjunto cuentan con la financiación

atienden de manera adecuada las competencias propias de cada uno

reflejada de manera correcta la señora berrojalbiz también ha hecho referencia a esta cuestión que me parece realmente también importante

esta ley solo fija una metodología para el reparto proveniente del producto de la gestión del concierto económico y como tal claro que tiene en cuenta todas las figuras tributarias concertadas

el reparto competencial actual y todos los niveles institucionales hemos convenido que esta es la mejor de las normas de reparto posibles en este momento por ello aunque

una mayor ponderación el treinta por ciento del esfuerzo fiscal es el porcentaje en que hemos convenido

que debo atenerme en conclusión y al igual que le he dicho al señor gordillo les pido también el voto favorable al menos

en su posición política en relación a esta ley que los demás entendemos que es tan favorable

por eso yo le pediría el voto favorable pero bueno ustedes decidirán en cuarto lugar debo

eh bildu es el único grupo parlamentario que al menos en las alegaciones no solicita la devolución del proyecto de ley sino la suspensión de su tramitación que se desarrolle una ley con una visión más amplia de todas formas los que han solicitado la devolución me imagino que tendrán un modelo alternativo

de tener un consenso suficiente como para ser aprobado en esta cámara también tengo mis dudas jakina denez pinedo andrea

hartu zen por ello mismo resulta falso señalar que se ha impuesto la mayoría sin haber alcanzado un amplio consenso y ello

para el ejercicio veintidós cuando nada tiene que ver alcanzar el consenso con la aprobación de los presupuestos del veintidós por el contrario

y aprobar los presupuestos del año veintidós precisamente con esta nueva metodología por otro lado el procedimiento para debatir y aprobar este proyecto de ley no debe posibilitar porque ninguna ley lo exige

sino sancionar un acuerdo alcanzado entre instituciones es decir entre los poderes ejecutivos ya que eso es lo que ha querido la ley de territorios y el propio estatuto puede estarse o no de acuerdo con el procedimiento pero es el procedimiento actualmente vigente

pero sin embargo olvida la conclusión general del informe lile en relación a la suficiencia financiera de los municipios

se lo he señalado al señor soto que las instituciones locales de euskadi en su conjunto

de sus competencias así como que la distribución del gasto entre los niveles institucionales de la comunidad autónoma de euskadi atiende de manera adecuada a las competencias propias

y su siguiente ley de metodología dado que tanto el consejo vasco de finanzas públicas como las instituciones ahí representadas también son destinatarios directos de las mismas

y consolidación de cuentas tampoco aquellas recomendaciones a los territorios históricos en relación con el ejercicio de sus competencias en materia de tutela financiera o las que puedan afectar a los consejos territoriales de finanzas en relación con la aplicación de los artículos ciento once a ciento quince

para terminar frente a las críticas por no tener en cuenta la voluntad de los ayuntamientos

que la voluntad municipal se exprese a través de la asociación con mayor representatividad y le puedo asegurar que el acuerdo ha tenido en cuenta la opinión de eudel no así como es entendible de todas y cada una de las entidades locales de euskadi

relativos a las políticas de promoción y planificación del euskera como para el fondo de servicios sociales recomendaciones ambas incluidas en el informe lile en cuya elaboración participó también eudel

el tono de su intervención dentro de su legítimo derecho a oponerse

y a la vista de una oposición rotunda al planteamiento de este proyecto yo le pediría con toda humildad también al grupo de bildu que haga un replanteamiento de la situación al igual que se lo he pedido al resto de grupos parlamentarios para que en base a estas aclaraciones nos otorgue un margen de confianza

a una ley de aportaciones que es enormemente positiva para las instituciones que estamos aquí también hoy y para el conjunto de ciudadanos que es evidentemente lo más importante

de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno sus intervenciones y su respaldo al importante consenso alcanzado entre las instituciones vascas con el fin de que todas y cada una de ellas cuenten en un reparto equilibrado con los recursos financieros suficientes para desplegar sus políticas de gasto

después de diez años de gestación nos la presentan deprisa y corriendo amparados por su mayoría absoluta como le he dicho antes y con la seguridad de que pase lo que pase saldrá adelante pero además con el voto negativo de todos los grupos de la oposición grupos que además nada tenemos que ver unos con otros pero que ustedes han logrado reunir en un clamoroso no

del acuerdo han logrado el consenso de la oposición consolidan con este proyecto de ley al gobierno vasco como la administración de las administraciones intermediario necesario

cada vez más dinero cada vez más opaco pero como no hay resistencia porque ya lo manejan todo no hay problema

la mejor ley de todas las posibles la ley que necesita este país pero qué país porque el país vasco es una comunidad no un país vamos a partir de esa base apuestan sin rubor por la centralidad de su gobierno restando peso a las provincias y a los municipios cada vez más y cada vez menos diputaciones y ayuntamientos cada vez más el dinero se gasta donde no hay contacto con el ciudadano y menos donde la relación con él es estrecha esa centralidad además que ustedes critican al gobierno de españa y la imponen ustedes aquí esa ley que ustedes van a aprobar hoy es la confirmación además de las desigualdades territoriales es la consolidación de las diferencias que crecen con el paso de los años

le preguntaba en mi primera intervención por qué han conseguido que algunos de los tributos directos que antes se repartían entre todos los territorios históricos

el impuesto que grava la producción energética ese ha sido uno de los puntos para poder acordar este proyecto de ley eso es algo que también no nos ha contestado y me interesaría saber el fondo de ajuste señor azpiazu no debería de aumentar

claro que álava y gipuzkoa son los que han posicionado su voto a favor de este incremento porque somos los que más desigualdad tenemos al contrario que lo que ocurre con el gobierno vasco y con la diputación

es un adelanto de lo que va a pasar en esta legislatura que siempre vamos a estar en contra de lo que ustedes hacen porque ustedes lo hacen a base de rodillo y poca

como le he dicho hoy han logrado reunir a toda la oposición en esta cámara al rechazo de su proyecto traído además por la puerta de atrás sin hacernos posible presentar enmienda de ningún tipo

una demostración de lo que para ustedes somos los grupos que osamos oponernos a sus pretensiones a sus obsesiones

jamás su acercamiento será mal visto por mi equipo jamás téngalo muy claro al contrario

gracias señor azpiazu y muchas gracias a la señora berrojalbiz

que el propio consejero pero vamos una cantidad de datos que yo la verdad que desconocía muchísimos de ellos

preguntado al gobierno pero no las he visto que les haya preguntado por esa vía no sé

supongo que tendrá pues no sé una cantidad de información

agradeceríamos que compartiera con el resto de grupos porque yo creo que el argumento principal de esto del debate que hoy nos ocupa aquí es el que hemos comentado es decir el proceso de negociación y el proceso al final de aprobación de esta ley que todos conocemos

no sé qué frase exactamente ha dicho pero ha dicho es que esto pone nerviosa la

creo también que es muy importante que hubiera sido muy importante

nos hubiera dicho a la comisión de economía el señor consejero en julio que quería comparecer y que nos explicara esto yo la verdad honestamente me esperaba que ese iba a ser el procedimiento la verdad

porque hombre el procedimiento habitual del gobierno suele ser siempre el mismo si se le hacen preguntas relativas a un asunto que considera que está en marcha dice que no que ya dará explicaciones cuando lo acabe si se le hace cuando ya está acabado dice ah no es que a usted se le olvidó preguntar antes hombre

ya se le pasó su derecho de preguntar pues hombre yo

sobre todo el tema fundamental señor azpiazu y usted yo creo que coincide conmigo es que el acuerdo al que se ha llegado en el consejo vasco de finanzas

tiene que ser por nuestra parte un acto de fe pero además en esto le tengo que reconocer que usted es sincero porque sus palabras estarán en el diario de sesiones o créanme que es el mejor acuerdo posible

porque desde luego con el análisis de los papeles que nos ha presentado hombre la ley de empleo público creo que son dos tomos

del sector público etcétera e incluso la brevísima ley de cuerpos y escalas pues trae una serie de informes que son muy completos entonces yo no entiendo por qué esta

así que es una cosa que me preocupa el hecho de que no vengan las leyes con la justificación oportuna yo entiendo que el grupo que soporta al gobierno pues no le pida explicaciones pero lo que pasa es que hombre de ahí de no pedirle explicaciones a casi casi le

que insisto yo agradecería que toda esa información que maneja ella pues que si la compartiera yo creo que sería muy positivo para esta cámara y para estos parlamentarios

que los parlamentarios tienen que defender al gobierno hombre no sé yo creo que los parlamentarios tienen que defender a los ciudadanos pero seguramente habré oído mal vamos a ver

la señora pérez ezquerra ha hecho un discurso corto breve ya se sabe

la verdad es que me ha parecido un discurso mucho más breve en el que la verdad pues intenta establecer un apoyo un apoyo al gobierno pero claro dejándole al gobierno que lo justifique se nos ha dicho varias veces en las distintas intervenciones

casi casi casi era un acuerdo no sé casi del pnv consigo mismo porque

entonces hombre esta metodología señor azpiazu que tiene usted no sé si la considera de negociar de traernos aquí ya un acuerdo cerrado

y no va a haber uno mejor y además si no lo votan favorablemente es que son ustedes unos desleales o tal pues hombre yo creo que así esto no funciona desleales no lo pongo en su boca le quiero decir que es que usted viene aquí

las que no está aportando la información necesaria que lo justifique la señora berrojalbiz por su profesión fuera de la política sabe

o tienen que tener un soporte de una cierta documentación hombre y aquí igualmente

con un cuadrito de estas características que esta es la información que nos aporta hombre yo creo que mejor se podía haber hecho desde luego tiene usted financiación en su propio departamento para hacerlo dice no es que no nos han preguntado nada haber preguntado antes oiga hemos recopilado casi toda la información que hemos podido la verdad de ahí pero claro ustedes esto en julio que por cierto le hacemos las preguntas nosotros

se toman poquito tiempo para contestar les mandamos las preguntas prórroga no sé qué al final las preguntas tardan muchísimo entonces claro usted está jugando hoy un poco al despiste no

comparezco no ya contestaré a las preguntas ha sido muy claro muy abierto muy transparente pues no es un tema tremendamente complicado como usted bien sabe el cálculo de los coeficientes los horizontales no los han tocado se ve que eso era un tema

para su propio partido y han tocado los coeficientes verticales que la verdad es que nos podían dado no sé algún tipo de explicación un poco más desarrollada no es que

el tema social no y luego sobre todo eso no no es que como van a aumentar las transferencias que hay que hacer a las diputaciones para el tema social pues tenemos que tener

si el dinero va a acabar en las diputaciones que son las que van a desarrollar tema social las competencias en materia social pues déjelo a las diputaciones es que esto se parece mucho a un cálculo a ojo la verdad

y luego vuelvo a insistir un afán acaparador de recursos cuando luego

vamos a ver en inversiones año dos mil veinte

vamos al dos mil diecinueve cincuenta por ciento se ejecutó solamente capítulo inversiones

cincuenta y siete por ciento de ejecución es que esto y nos podemos seguir retrotrayendo entonces hombre y el argumento que me dice usted es que es un argumento falaz creo que no ha dicho usted falaz

hombre el argumento que se utilizó en la anterior ley de dos mil siete lo decía claramente decía no no como se pasaba

decía la ley decía esto es una traslación de recursos a las entidades locales hombre pues aumenta si reducir el coeficiente es una traslación de recursos a las entidades locales o lo que fue en el momento pues hoy día aumentar el coeficiente

no no me dice que no pues oiga pues nada nada oiga la argumentación

a lo mejor le oímos en algún foro en los que se predica usted y además lo hace muy bien y yo soy fiel seguidor suyo y a lo mejor ahí lo consigo entender mejor pero le insisto seguro que es un tema mío que

señor azpiazu será una ley de aportaciones o será la ley de aportaciones que cuente con el menor apoyo de esta cámara me podrá criticar a mí criticará también a la señora pinedo señora martínez pero en fin

yo creo que los argumentos que se repiten son parecidos son parecidos

pero una ley de aportaciones que sea clara que sea transparente y donde los ciudadanos las personas tengamos evidentemente la garantía

tiene que ver con cargas con gastos con compensaciones por competencias desarrollo de ciertas cuestiones sociales y no que en una habitación cerrada nos hemos encerrado y venga es que bizkaia ahora tiene mucho tiene un poquito es que gipuzkoa ahora hay que compensar es que a álava hay que compensarla por otro lado pues venga

claro mover una décima de esto es mover algunos cientos de millónes como usted sabe algún ciento de millónes por eso nuestro grupo se opone

nos oponemos pero lo hacemos de buenas para que esto se reelabore y sobre todo para que se nos aporte la información es que a nadie le cabe traer una ley así sin más alterando algo tan importante como los coeficientes no no hay que preguntar en su momento oiga yo creo que ese argumento se cae por su propio peso pero el problema es que esta metodología llueve sobre mojado señor azpiazu porque enseguida tenemos los presupuestos

que serán los mejores los más sociales los más igualitarios los de la recuperación si ya le hago yo aquí el discurso y luego dirán o lo toman o lo dejan y si no lo toman oiga pues

por eso nos negamos señor azpiazu y por eso mantendremos nuestro voto

gracias señor consejero por las explicaciones que nos ha dado

a la portavoz del partido nacionalista vasco o a usted porque básicamente han compartido buena parte de los argumentos

yo voy a empezar igual por la parte final lo que comentaba el señor

yo la verdad es que en este sentido y será una excepción seguramente en el histórico de esta cámara pero estoy de acuerdo con él yo estoy bastante convencido de que si no tenemos

en realidad el motivo por el que se han fijado es más un equilibrio político

cerrado y del que poco sabemos en cuanto al contenido de esas conversaciones y no tanto a un análisis pormenorizado que si hubiese sido así pues seguro que hubiese venido acompañado del documento que hoy nos presentan las razones por las cuales

del uno por ciento al uno coma cuarenta y cinco por ciento del fondo de compensación o del setenta

o el treinta y nueve por ciento de coeficiente mínimo de cara a los municipios que entendemos que esto hubiese venido probablemente muy bien justificado

parece un poco en fin derivar así la responsabilidad de que elementos tan sustanciales

si llevan diez años tirándose la sí sí el documento está pero la justificación y las razones por las cuales se aplican estos porcentajes no

que si es así también esa razón de que los desequilibrios territoriales en términos de evaluación de origen es decir partiendo de un análisis previo de los desequilibrios territoriales o también por ejemplo de los

en la medida en que hay un desequilibrio en función de los proyectos de los fondos europeos que acoja a cada territorio o

que pudiese ser compensado mediante los porcentajes de reparto así como con las competencias así como con la situación de los

que tienen menor capacidad normativa en cuanto a lo que se refiere a los ingresos y que además en lo que respecta también al elemento del riesgo compartido ha sido motivo de queja cómo les ha influido a los municipios a razón de la última crisis

de la pandemia y posteriormente de la rebaja del entorno al quince y el veinte por ciento de sus ingresos por las diputaciones entendemos

ayuntamientos salen más perjudicados en el sistema de reparto es una evidencia no solo en euskadi es verdad que en el resto del estado es

refleja ya de inicio porque es el criterio base sobre el que se articule el reparto que el pib refleja las diferencias de renta

utilizar este criterio como usted compartirá seguro es un criterio regresivo o sea creemos que plantear que

único o fundamental de reflejo de las diferencias de renta entre los territorios

no es para nosotros el que debiese de ser y efectivamente igual se corresponde a un elemento doctrinal no lo sé pues también para eso estamos aquí para cuestionar elementos de base

de políticas diez años de retraso no creemos que sea

son diez años de retraso con motivo de las muchas negociaciones que se han tenido que dar en el ámbito de los diferentes gobiernos que obviamente pues quieren mantener la suficiencia financiera

algunos de ellos vienen años no disponiendo de ella y quejándose de esa cuestión pero creemos que el hecho de que

es porque básicamente no había la capacidad de concitar en un mismo espacio

a representantes de gobiernos de diferentes instituciones que reflejan una mayoría muy clara en la que el pnv es el elemento preponderante como cuando se habla

aparte de que los informes en los que se está basando continuamente el gobierno en relación para sostener

que son informes ciertamente bastante obsoletos porque es verdad que uno es del dos mil dieciocho basándose en datos del dos mil quince

los datos actuales que reflejen que efectivamente la financiación de los municipios es suficiente ya le digo

que a día de hoy lo sostengan más allá de mayorías muy interesadas en determinados órganos no vamos a poder compartir ni cambiar de posición al respecto de nuestro voto

y que usted tal vez considere más de forma que de fondo y es

no está justificado y motivado buena parte de los cambios

y además es que consideramos que se mantiene lo que es un desequilibrio territorial a la vista del alza del fondo de compensación que es asumir que va a haber de suyo siempre

no de origen a posteriori y que a priori no vamos a aplicar criterios que corrijan esos desequilibrios o en su caso si se aplican bueno pues que sean

lo que luego acaba siendo lo que motiva el uso del fondo de compensación o sea lo que acaba siendo motivo del uso de compensación son ciertos desequilibrios que no se acogen ni son indicadores que se reflejen en la ley de aportaciones por qué

no debe ser así no se ha venido haciendo

poder cambiarlo por tanto bueno pues simplemente incidir en lo que ya le he dicho que mantendremos nuestra posición y que desde luego nos hubiese encantado y nos hubiese gustado que hubiese sido otra

diálogo y no desde luego solo estar a la expectativa para iniciar ese diálogo en base a las preguntas que formulen los grupos parlamentarios en esta cámara si no preguntamos pues

yo puedo entender que hoy se quieran aquí subrayar por parte del gobierno y los grupos que sustentan al gobierno que esta ley

que hay un aval unánime creo que me acabo de explicar respecto a ese aval unánime que aporta estabilidad financiera incluso en algún momento alguno de los representantes ha dicho

menos mal que el consejero luego viene a matizar como habitualmente suele decir y dice que quizás esta ley no satisface a todos los niveles institucionales

matiza las frases de algunos de los grupos que sustentan al gobierno qué telita telita

pero es que el diálogo y el entendimiento y acuerdo después de diez años donde las instituciones de este país han puesto en sucesivas ocasiones

de la ley de aportaciones que estaba en vigor y que resulta que el diálogo y entendimiento y el acuerdo llega oh sorpresa

en esta institución pues permítanme que el diálogo el entendimiento y el acuerdo lo pongamos en cuarentena que últimamente utilizamos bastante esa palabra se ha hablado de la ley de territorios históricos de si es legítima o no es legítima menos mal que luego ya se ha hablado de que eso

por parte de mi boca no ha salido nada a ese respecto pero por lo menos tendremos por lo menos tendremos el derecho de quizás estar en contra

la lth por ejemplo y por eso mismo también décimos que estas leyes de financiación

de todos los niveles institucionales hoy se ha vuelto a decir en repetidas ocasiones

recordaba aquella comparecencia del consejero cuando vino a explicar aquel informe lile y recuerdo perfectamente mi intervención y yo fui clara en el aspecto de decir que bien recogíamos aquel informe pero éramos muy críticos con las conclusiones generales de aquel informe

porque aquel informe desde el inicio del propio informe que no iba a analizar el uso de las competencias duplicidades o la correcta asignación de recursos

para las competencias correspondientes si ese era el origen de qué estamos hablando o sea dónde está que esas conclusiones son

tienen suficiencia financiera cuando no se entra a hablar de las duplicidades de la correcta asignación de recursos entre las distintas administraciones

podemos alabarlo podemos utilizarlo como se considere oportuno como se ha dicho yo leérmelo me lo leo y lo analizamos en aquel momento pero sinceramente no se puede hacer

pero nosotros tenemos claro que aquella lectura que hicimos cuando vino el consejero a explicarlo con dos años y pico si no me acuerdo mal de retraso respecto a lo que indicaba la ley

sea dicho lo seguimos manteniendo y nos sigue dando la razón se nos dice que de dónde sacamos que las entidades locales edo udalek ez daukatela finantzazio nahikoa nik ez dakit zein udaletan ibili izan zareten zuok

de alerta temprana que realiza eudel siempre siempre siempre de la falta de análisis de la financiación y de los recursos de los municipios

constantemente en todos sus informes de alerta temprana tiene que dejar esta frase escrita

miren cuando se habla de que era el momento de que las circunstancias han llevado a este acuerdo y creo que

lo ha dicho yo en mi primera intervención lo he dicho se puede vestir al santo como se considere oportuno

pero han pasado diez años en donde hemos escuchado a diputaciones clamar clamar con problemas de financiación

de muchos colores incluso recuerdo un diputado general que se negó a respaldar en un consejo vasco de finanzas un acuerdo en relación

creía que su diputación estaba maltratada sin entrar a valorar si es correcto o es incorrecto pero eso ha pasado no durante estos diez años incluso

de vencimiento por lo tanto no digamos que todo ha ido miel sobre hojuelas porque

que todo es perfecto que la financiación de las instituciones de este país es la que tienen que ser que todos tienen una financiación suficiente entonces por qué ha habido

durante diez años para acordar una ley de aportaciones qué pasa que era un capricho de las instituciones que no sabían que tenían suficiencia financiera ellos y resulta que sí la tenían pero protestaban

porque les parecía que había que protestar porque incluso insisto diputaciones gobernadas por el pnv han llegado a mostrar esos desacuerdos por lo tanto sinceramente negar una evidencia me parece que algunas veces no nos ayuda yo entiendo que quieran alabar las bondades de esta ley lo entiendo

me parece fantástico pero insisto veremos otra vez cómo

problemas entre las diferentes instituciones porque no es la primera vez que ocurre

es que esto no es nuevo es que llevamos cuarenta años con esto y por eso algunos llevamos mucho tiempo diciendo que hay que abordar la financiación de las instituciones de otra manera y si tiene que ser con algo relacionado a la lth tendrá que ser

las leyes porque se hayan aprobado en este parlamento que evidentemente están en vigor sí que están aprobadas en este parlamento sí pero no las sacralicemos porque ustedes

les dicen a otros que no sacralicen la constitución por lo tanto

que se aprueban en este parlamento e insisto sacarán ustedes esta ley

dirán que es un acuerdo entre los tres niveles institucionales de este país pero muchos ayuntamientos de este país van a seguir teniendo problemas de financiación

van a seguir teniendo problemas para atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de sus municipios y ustedes dirán que es un gran logro pues miren como decía aquel la perra gorda para ustedes pero los problemas van a seguir

se ocupan de la recaudación tributaria en el estado no ocurre eso no porque existe

en un pequeño territorio existiendo como existen tres haciendas con un importante poder tributario y la facultad de recaudar

claro quién ha dicho que no haya desajustes pero a lo largo de los años estos desajustes

dispongan de la suficiencia y estabilidad de suficiencia y estabilidad económica porque nadie ha dicho señora pinedo que no haya cosas que ajustar porque

un acuerdo interinstitucional diputaciones tres diputaciones

eudel y el gobierno vasco y es el mejor acuerdo que se ha conseguido entre diferentes partes que cada uno pelea por lo suyo y en un acuerdo hay que dejar cosas en el tintero hay que saber ceder pero claro ustedes son más de líneas rojas y lo de ceder pues no va no va con ustedes

lo suyo sin atender a lo aportado por otros grupos en mi caso y de hecho eh bildu se sigue reafirmando en su crítica por la manera de proceder con los ayuntamientos yo le diría como dato que debido a la última ley municipal el estatus que los ayuntamientos han tenido en el consejo vasco de finanzas y no me lea titulares o sea yo me voy a la ley ha aumentado y que cuentan ya con su propia representación antes alguien ha dicho que en el consejo vasco de finanzas solo hay representantes del partido nacionalista vasco pues tampoco porque en el consejo vasco de finanzas también hay

algún alcalde de eh bildu por tanto los ayuntamientos tienen un estatus propio en el consejo vasco de finanzas con independencia de lo que diga la señora pinedo

pero también el nivel municipal de hecho señal de ello es el mínimo de financiación municipal fijado en un treinta y nueve coma veintinueve que ha sido una reivindicación que hacía eudel

respuesta integrándolo en esta ley que por cierto

lo decían sus alegaciones sí es superior municipal en términos homogéneos al cincuenta y cuatro coma siete previo y no solo que sea superior para lo que le invito a revisar los cálculos disponibles porque nuestros compañeros en juntas generales han hecho una solicitud de información y los junteros y por tanto con información pública se puede verificar toda esta información o sea no es una información que yo exponga por ser un partido que sustente al gobierno sino es una información pública por tanto si buceamos un poquito tenemos información

y no solo que sea superior por la verificación de esa información que está disponible en las juntas generales sino que además

con lo que la lectura del partido nacionalista vasco no puede ser más positiva y es por ello que también me gustaría hablando de temas municipales me gustaría poner en valor la incorporación de los

con un capítulo especial dedicado a la financiación municipal yo señora

he dado constataciones derivadas del informe lile he dado datos sobre capacidad

de las diferentes instituciones nada más constataciones yo no he visto ninguna por su parte ninguna constatación yo he cogido me he cogido el informe lile y he dado datos

y ahí tendrá mis palabras porque es más fácil ya veo que hacer desde este estrado este tipo de reivindicaciones pero

siguen también sí siguen también defendiendo por lo que mantiene en sus intervenciones que era necesario cambiar

eso es lo que ha advertido en algunas de sus posiciones pero en cambio no observo

pero en qué qué es lo que se ha de cambiar sustancialmente en la ley cuando hoy se presenta una ley que incorpora todas las recomendaciones del grupo de expertos del informe lile

cuando se aumenta el fondo de ajuste y cuando se incorpora la reivindicación de los ayuntamientos blindando su mínimo de financiación municipal por ley

han puesto encima de la mesa una serie de conceptos batiburrillo de aspectos de valoraciones con grandes titulares pero no le veo que tengan mucho soporte pero bueno es su marca y bueno diría también

no atienden a mis explicaciones de porqué sube el vertical y por tanto no voy a ahondar en las explicaciones que ustedes no quieren escuchar lo he intentado en mi primer turno pero veo

dudarik gabe ekarpen lege proiektu honek porque el valor de lo acordado radica

se presumió complicado acuerdo que nos va a permitir centrarnos en la recuperación tal y como lo ha dicho el consejero azpiazu porque se trata de un hito fundamental para afrontar unidos y desde una base firme el proceso de recuperación económica y el empleo

en la estabilidad para responder a los retos de las transformaciones globales que euskadi afronta como país ecológica y energética

el acuerdo en torno a la ley de aportaciones marca un hito y permitirá a todas las instituciones vascas arrancar el uno de enero del dos mil veintidós con unos presupuestos asentados en la certidumbre permitirá centrarse en la recuperación económica y la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad esta

compartimos con las instituciones vascas en un modelo de colaboración con el tejido cooperativo y empresarial un acuerdo que se ha logrado en el curso de numerosas reuniones técnicas

del consejero y todo el departamento de hacienda junto a las tres diputaciones forales y la representación de los municipios vascos por tanto un acuerdo sin duda

de acuerdo y siempre con una visión de país euskadi y eso es lo que nos queda por nuestra parte

buenos días a todos señorías bien este punto yo creo que va a ser breve en comparación con el anterior y nosotros lo que tenemos que hacer es justificar nuestra firma junto a los grupos el grupo nacionalistas el grupo socialistas

de ley de modificación de la ley once barra dos mil diecinueve de cooperativas de euskadi tenemos que decir que algunos trabajamos con dedicación

de euskadi fuese una realidad en la pasada legislatura y que

supusiese una mejora una modernización de este sistema empresarial de economía social que se ha desarrollado de una manera tan potente y tan ejemplar en nuestra tierra recordemos a treinta de junio de dos mil veintiuno en el país vasco existen tres mil cuatrocientos dieciséis cooperativas quinientos veintiocho en álava

de todos los tamaños y enfocadas en muchos sectores en casi todos los sectores en este momento tecnológicos productivos en nuestro país ayer mismo comprobábamos en san sebastián en el acto celebrado con motivo de la entrega del premio denon artean promovido por el consejo superior de cooperativas de euskadi y otorgado a la alianza cooperativa internacional aci cuál es

no solo en nuestra comunidad sino también en el ámbito español en el ámbito internacional y por eso debemos de trabajar en este parlamento por que la normativa reguladora de este sector esa normativa esas leyes faciliten el hecho de que puedan seguir desarrollándose de que puedan seguir creciendo

de que todo ello genere además más empleo y más riqueza económica como ha demostrado hasta la fecha la ley del ochenta y dos de este parlamento la ley del noventa y tres y sus reformas y la ley de

que aprobamos al final de la legislatura pasada pues ha tocado pronto pero ha tocado reformar también esa ley sobre cuestiones técnicas

en la proposición de ley en la exposición de motivos los grupos firmantes exponemos las características de la reforma que se refieren al ámbito de las cooperativas de seguros en ese sentido el acuerdo de la comisión bilateral de cooperación administrativa

de adecuación de los artículos ciento veinticuatro punto uno y ciento veinticinco punto tres de nuestra ley a la normativa general sobre entidades aseguradoras también

sus estatutos y las cuestiones registrales aun a la nueva ley después de las consecuencias a todos los niveles a todos los niveles sociales

y por ello la necesidad de aumentar ese plazo de adecuación estatutaria hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés y también importante es la posibilidad

de adaptación al uso de los medios y de los métodos telemáticos electrónicos de los diferentes órganos en las cooperativas

las comisiones los órganos de todo tipo y siempre pues adaptar ese uso telemático su uso electrónico

y más en ese ámbito de relación interpersonal que son las cooperativas y de unión en común pero en cualquier caso todo esto tiene que estar

hay que adaptarlas bueno todos cuestiones como esta telemáticas y electrónicas también este parlamento hemos podido conocer y a las que nos hemos tenido que adaptar con la reforma del reglamento pues mucho más también en este ámbito tan dinámico

empresas cooperativas también ha habido que corregir algún error material la traducción al euskera o en la identificación de referencia errónea

que también se integran en esta proposición de ley ese es el propósito de la proposición y de las modificaciones propuestas de acuerdo con la normativa general

circunstancias a las nuevas necesidades este parlamento se ha caracterizado de economía social y en materia de regulación de normativa cooperativa por un amplio acuerdo a la hora de regular y de analizar la economía social y su expresión más implantada

de cooperativas y economía social con la presentación del plan estratégico encargado al gobierno sobre economía social

el cooperativismo es una realidad reconocida en europa ayer lo comprobábamos también cómo un factor económico clave con un factor económico y social

y según las previsiones que ayer se ponían de manifiesto también en euskadi

al final de esta década el veinte por ciento del empleo será de economía social

el cooperativismo y nosotros lo podemos hacer adecuando la normativa e impulsando la acción del gobierno en su fomento y

la economía social ha aguantado mejor el embate de la crisis que estamos viviendo mejor que otras fórmulas económicas pero está claro que también se ha visto afectada y por ello se ha visto la necesidad de modificaciones en este caso en su expresión cooperativa y es lo que hemos hecho los grupos firmantes

realmente en comparación con el punto anterior cualquier punto puede ser mucho más breve vamos a ser breves porque hay un acuerdo yo creo que muy amplio

de utilidad a la ciudadanía vasca con lo que vamos a hacer en este parlamento habiendo sido cómplices entre todos nosotros de elaborar

de un sector que es estratégico para euskadi como es el sector cooperativista y en base a establecer esas complicidades pues poder dar una respuesta rápida a aquellos problemas que nos han planteado

en el premio del cooperativismo vasco que se denomina denon artean y yo creo que este es un concepto bastante importante y muy potente porque además hoy juntos

vamos a establecer con diálogo con acuerdo una respuesta a esos problemas que nos han planteado como saben en el año dos mil diecinueve

la ley de cooperativas y desde ese año han pasado muchas cosas unas tienen que ver con la pandemia y otras no la primera de ellas es que como saben

en el boletín oficial del país vasco desde el gobierno de españa se advirtió al gobierno vasco que habíamos incluido una figura

nacional en ese momento se estableció un proceso de colaboración entre el gobierno vasco y gobierno de españa para llegar a un acuerdo

la figura de las cooperativas de seguros que operan

de nuestro ordenamiento jurídico haciendo que solamente sean las que

hoy en esta proposición de ley y luego cosas que tienen que ver como he dicho con la pandemia la primera de ellas es que

para que hicieran las modificaciones estatutarias necesarias para adecuarse a esta nueva ley claro ha pasado lo que ha pasado y evidentemente las cooperativas han tenido muchos problemas

a este requisito entonces nos parece lógico nos parece normal

esta fecha de cumplimiento y eso lo recogemos también en esta proposición de ley pero además ayer oíamos en ese acto

que la sociedad cambia y evoluciona constantemente algo que es evidente y que el ámbito de la innovación el ámbito de la tecnología tenía que tener su

de las cooperativas sino también al ámbito de la organización interna y hoy vamos a incluir con esta proposición de ley esa posibilidad no la posibilidad de que los cooperativistas decidan recoger dentro de los estatutos de sus cooperativas

se puedan llevar a cabo reuniones telemáticas de sus diferentes órganos estableciendo diferentes condiciones lógicamente según sea el órgano y estableciendo una garantía un derecho que nos parece muy importante y es el de que si hay un cooperativista que quiere seguir estando presencialmente en la asamblea

a quienes puedan ser siempre los más débiles decía que denon artean es un concepto muy potente y es un concepto que define muy bien al cooperativismo pero define también muy bien el proceso que hemos utilizado para llegar hoy aquí a este parlamento en primer lugar

de trabajo y empleo analizando cuáles son las necesidades y qué problemas han encontrado después de la pandemia incluso en el cumplimiento de las propias leyes

esas reflexiones que se ha hecho con el mundo de las cooperativas y haciéndonos partícipes de la búsqueda de la solución todos nosotros los grupos parlamentarios

ellos están de acuerdo con adoptar esas soluciones y además llegando al acuerdo

el que le demos a esta proposición de ley para garantizar que lleguemos a tiempo y yo me quiero detener un momentito en este punto para agradecer la actitud que hemos tenido que han tenido todos los grupos parlamentarios porque con independencia de lo que hoy se vote en esta cámara es cierto que si hoy estamos aquí es porque la unanimidad la unanimidad

desde el grupo mixto vox pasando por el grupo popular pasando por el grupo podemos pasando por el grupo socialista el grupo eh bildu y el grupo nacionalistas vascos hemos decidido que se pueda abordar por el procedimiento de lectura única y yo creo que esto es nosotros como grupo socialista siempre vamos a estar en la defensa de un sector que es estratégico para euskadi estamos en ello agradecemos que haya habido mucho consenso para desarrollarlo y creo que es un ejemplo para seguir en este camino nada más y gracias

apustua egiten du zalantzarik gabe apuesta que se materializa en claras estrategias que persiguen superar los efectos negativos de la pandemia estrategias

la inversión la innovación y la internacionalización es cierto la pandemia ha tenido un claro impacto negativo en la economía y en el empleo en euskadi

pero adaptándonos a los nuevos retos y a las nuevas realidades con las que nos enfrentamos una de estas estrategias esenciales para reactivar recuperar y mejorar la calidad del empleo se materializa en el compromiso de este gobierno de reforzar el papel de la economía social

apoyando el desarrollo de las empresas de economía social facilitando actuaciones dirigidas a reforzar su dimensión incorporar nuevas personas socias y fomentar la intercooperación y el asociacionismo entre ellas apoyando también

social corporativa incentivando así mismo

y para hacer todo ello es necesario desarrollar la ley de cooperativas de euskadi como ya estaba previsto entre los compromisos de este gobierno

que a pesar de ser del veinte de diciembre de dos mil diecinueve necesita una concreta adecuación porque es muy importante contar

y a necesidades urgentes respuestas rápidas lo que traemos hoy a consideración del pleno va precisamente de esto de saber escuchar

posible para dar respuesta a las demandas de la sociedad en este caso a las demandas y preocupaciones expresadas por el mundo del cooperativismo esta es también

si bien es cierto que la ley de cooperativas es una ley reciente no es menos cierto que la crisis sanitaria que hemos vivido con la pandemia ha dejado al descubierto también en este ámbito alguna limitación legal que es necesario corregir hablamos en este caso de dos aspectos no previstos del todo en la normativa en vigor

una concreta utilización de esos medios telemáticos en las reuniones de los órganos colegiados y la moratoria para adaptar los estatutos de las cooperativas a esta misma ley dos cuestiones sobrevenidas dos necesidades que requieren

dos demandas que el propio sector nos ha trasladado y a las que como se ha comentado hemos buscado la fórmula y el procedimiento reglamentario en esta cámara

ante dos modificaciones que van a facilitar a las cooperativas por un lado a adaptar sus estatutos en un plazo de tiempo razonable teniendo en cuenta la parálisis a la que

de una forma más eficaz y eficiente nada extraordinario pero nos exigía una actuación rápida como la que estamos ofreciendo las cooperativas nos han demostrado en estos largos y duros meses que tienen muchas fortalezas en su modelo sus principios basados en la solidaridad la gestión participativa o la cooperación han permitido una reacción positiva impulsando en muchos casos iniciativas nuevas y ajustadas a la realidad de lo que estábamos viviendo han resistido nos han demostrado la fuerza que tienen y

una nueva fase con el reto de recuperarse cuanto antes y de la mejor manera posible

también desde aquí y demos una respuesta positiva a sus planteamientos kooperatibek beren indarra erakutsi dute eutsi egin diote ez arazorik gabe

lagunduko diegu eguneroko funtzionamenduan lagunduko diegu esto es lo que con esta reforma hacemos solo me queda animar

nuestra propuesta que es en definitiva la propuesta del sector eskerrik asko

se ha debatido una iniciativa para subsanar las discrepancias competenciales entre el gobierno de españa y el gobierno vasco en torno a la ley de cooperativas de euskadi

subsanación de errores y contextualización de la ley aprobada en dos mil diecinueve

la situación generada por la pandemia del coronavirus ha afectado al normal funcionamiento de las cooperativas y en concreto a la posibilidad de que sus órganos cooperativos

en primer lugar por estar fuera de sus estatutos fundacionales y en segundo lugar por la no disponibilidad de medios electrónicos suficientes la experiencia adquirida a lo largo de estos meses nos ha enseñado que las videoconferencias o reuniones telemáticas han llegado para quedarse

forma de interactuar en esencia el procedimiento sigue siendo el mismo y lo único que cambia ahora mismo es el mecanismo

y la moratoria que pretende esta proposición de ley hasta la fecha del cierre del ejercicio ordinario de las sociedades el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés creemos que es razonable

cuestiones que desde vox entendemos razonables y así lo expresamos además abiertamente y sin complejos muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos

ibiltzen dela son dos imágenes y muchas veces se dice que dos imágenes valen más

y vienen a decir lo mismo básicamente que esto todo esto es fruto de la precariedad extrema de la precariedad laboral y que los riders tienen derechos laborales y necesitan derechos laborales dignos que el empleo siempre y sin ninguna duda tiene que ser digno muturreko

un problema y es que no se puede emprender para implantar condiciones nefastas realmente creo que deberíamos hacer hincapié en esto y empezar a hablar de ello no se puede emprender de cualquier forma si tu idea se basa en la explotación de las trabajadoras de la empresa que te quieres montar esa idea

no podemos seguir hablando de emprendedores que se han financiado y han

si lo que plantean consiste en reproducir el capitalismo salvaje y la explotación

pero con palabras en inglés como startup o algunas cuantas más y el problema sabemos cuál es que de alguna manera esa explotación está legitimada arraigada y muchísimas veces asumida en todos nuestros espacios eta esango nuke

ez diren jasotzen quiero explicar porque nosotras no vamos a apoyar esta transacción nosotras no podemos apoyarla porque se hace referencia a la mesa de diálogo social y además se quiere decir que la ley gracias a la mesa de diálogo social y no se puede entender esta ley sin las conversaciones y las reuniones previas con las plataformas o asociaciones de

otros sindicatos por ejemplo igualmente en esta mesa no están representados todos los sindicatos y tampoco se sientan las plataformas de riders

los que justamente son los que más saben del tema los que más sufren del tema y los que más tienen para aportar por ello como comentaba ayer también

pero la ley obedece tanto a la mesa de diálogo social como a otras muchísimas cuestiones para nosotras lo relevante es que se establezca la relación laboral entre las repartidoras

pero desde luego con esto no es suficiente y esto lo dicen las asociaciones y los propios afectados los riders más de una vez como nos han podido comentar

quedan totalmente relegadas a este acuerdo otras peticiones y exigencias hechas por las propias trabajadoras

diálogo social nos parece que no es la panacea no se representan la inmensa mayoría de peticiones e intereses de los riders poner como línea roja y desdibujar un acuerdo

no es una opción nos habéis tenido en vilo hasta el último momento creía de verdad que iba a conseguir mi primer acuerdo con el gobierno no ha podido ser aún y todo

vamos a respaldar esta transacción en los otros puntos horregatik puntuka

en tres puntos bien definidos punto uno las plataformas digitales desde nuestro punto de vista no son ni buenas ni malas

sino simplemente nuevos modelos de negocio que surgen por la evolución natural de la economía

y los problemas que tenemos con ellas son consecuencia de que la legislación no ha sido capaz de regular esta realidad a tiempo es que la economía como todos saben está en cambio continuo lo mismo que la tecnología y lo mismo que los hábitos sociales continuamente surgen nuevos modelos de negocio a la vez que desaparecen otros aprovechando las oportunidades que ofrecen la tecnología

esto es normal es síntoma de una economía sana y dinámica y abre oportunidades nuevas de empleo y de generación de riqueza como es lógico los nuevos negocios aprovechan los avances tecnológicos para dar respuestas

y por tanto conviene que seamos conscientes de que todo el proceso comienza por la conducta del consumidor

pedir comida a casa y queremos que nos llegue pronto y que no sea muy cara

todos buscamos en google los artículos del mejor precio en ese momento cuando lo hacemos no estamos pensando

y este es el origen del asunto la economía colaborativa es un nuevo modelo de negocio basado en las nuevas tecnologías mediante las cuales

pueden interaccionar al mismo tiempo con el fin de satisfacer unas necesidades

y dentro de este sector encontramos una variedad bastante grande de realidades empresariales de forma

no es el único por ejemplo el software libre es un modelo de economía

o las plataformas de artículos de segunda mano me atrevo a asegurar que en el futuro asistiremos a la aparición de muchos más negocios basados en la tecnología en diferentes sectores

sino como ya he dicho una consecuencia del dinamismo de la economía de la evolución de la tecnología y del cambio de hábitos de la sociedad empieza la iniciativa que hoy estudiamos hablando de forma simplificada de la uberización de la economía

uber se dio cuenta de que el noventa y cinco por ciento de los trayectos en coche lo realiza solo el conductor

de entrada qué tiene de malo esta iniciativa que ofrece una posibilidad de transporte barato y reduce la emisión de carbono a la atmósfera nada es cierto que colisiona

el problema surge entonces cuando los legisladores entre ellos nosotros

en tiempo y forma a las demandas de ese cambio regulando adecuadamente

los legisladores hemos llegado tarde a la nueva realidad de la economía colaborativa

ha tenido consecuencias ha provocado desigualdades problemas y vulneración de derechos se ve muy claro si miramos el calendario las primeras iniciativas de economía colaborativa

en dos mil diez y la primera regulación modificando el estatuto de los trabajadores ha llegado en dos mil veintiuno once años de retraso once años de problemas y dificultades

por haber dejado desatendidos tanto tiempo un sector sin regular lo que ha generado repito desigualdades y vulneración de derechos

han trabajado bajo el régimen de autónomos pero con unas condiciones que se asemejan al de los trabajadores por cuenta

y vulneración de derechos de los consumidores que no han tenido forma de reclamar

no podemos por tanto culpar al sistema económico o a la sociedad de lo que es absoluta responsabilidad legislativa hemos llegado tarde

setenta judiciales contradictorias es porque hemos obligado a los jueces a hacer sentencias sin el respaldo legislativo suficiente y esto que también nos ha pasado durante la pandemia pues efectivamente siempre produce el mismo efecto así las cosas

presentan un conjunto de beneficios y un similar al conjunto de desventajas

como todas beneficios como que cubren demandas de usuarios que antes no estaban cubiertas

que aumenta la demanda de los consumidores que genera empleo que se genera riqueza económica

pero claro que tienen desventajas las cosas nunca son ni blancas ni negras como que puede darse competencia desleal con sectores tradicionales que los derechos de los consumidores están desprotegidos por falta de regulación

precarización laboral y que además puede haber riesgo de evasión fiscal de algunas empresas bueno ventajas e inconvenientes por tanto intentar demonizar este tipo de empresas

de poner puertas al campo y no es más que un ejercicio de conservadurismo señores de bildu en algunos temas como este ustedes son más conservadores que vox es un ejercicio de rigidez

la actitud constante de este tipo de empresas para evitar las normas no es cierto son negocios nuevos que surgen en un entorno legislativo viejo simplemente

punto dos este es un tema ya resuelto a través de la aprobación en el congreso de los diputados del decreto

en cuyo debate ya dejamos claro que consideramos que la modificación del estatuto de los trabajadores era necesaria para que se regulase un tipo de trabajo que el estatuto hasta ese momento no recogía a ser una forma de trabajo novedosa

porque con esa fórmula se eliminó el debate parlamentario y las aportaciones de los grupos sobre un tema tan importante y tan necesario

por cierto bildu el autor de esta iniciativa no presentó ninguna enmienda

en todo caso fruto de esa regulación algunas empresas han cesado su actividad en españa por considerar

y con ello se han perdido miles de empleos miles de contratos para proveedores

tengo la sensación de que no lo hemos hecho del todo bien y último y punto tres

de que alguna empresa está cometiendo algún delito alguno se ha mencionado aquí hoy

pues obviamente lo que tiene que hacer es acudir a los juzgados y denunciarlo

y sin pruebas contra todo un grupo de empresas o contra el propio gobierno vasco

malas o culpables sino que la regulación legislativa

de los nuevos modelos de negocio y que ese es un asunto ya resuelto por el decreto nueve barra dos mil veintiuno y que si se considera que alguien incumplió la ley

nuestra coalición cuando hablamos de derechos de las y los trabajadores nada será suficiente desde luego para quienes hemos venido a la política

derechos de las y los trabajadores mientras vivamos en un sistema que se basa en la explotación del ser humano por el ser humano el sistema capitalista nosotros creemos que debatir una iniciativa como decía

en el día del trabajo decente relativa a los derechos de las personas trabajadoras y en este caso de las personas que hemos venido denominando

estábamos de acuerdo con lo que se nos proponía y hacíamos una enmienda a la totalidad añadiendo una serie de elementos entre ellos señalar a algunas de esas empresas a las que el señor

que demonizamos sin motivo alguno nosotros creemos que se ha alcanzado un buen acuerdo creemos que

es un avance en una lucha que es larga en la defensa de los derechos de las y los trabajadores una lucha que no se resuelve desgraciadamente en un solo día y que efectivamente compartimos que tiene todavía

porque nosotros pensamos que la inconformidad con la suficiencia de las medidas que se puedan tomar en este sentido y me refiero

va a ser compatible siempre en nuestro grupo con la defensa impepinable de lo que consideramos victorias para la clase trabajadora

que ese real decreto esa llamada ley rider ha sido una gran victoria una victoria que efectivamente yo comparto no responde solo al producto de la mesa de diálogo social nosotros en eso estamos de acuerdo pero creo que es también incuestionable que la mesa de diálogo social

patronal y sindicatos y que el resultado que es lo que a nosotros nos importa es un resultado positivo porque es un resultado de avance en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y por lo tanto es una conquista

siempre vamos a reivindicar y a defender esas conquistas que se puedan conseguir para la clase trabajadora reconociendo que todas proceden en última instancia desde luego de la lucha de las y de los trabajadores

de nuevas formas o novedosas formas de organización que han venido llevando a cabo como se decía entre otras cosas porque por su propia situación tenía muy complicada

sindicales más clásicas nosotros pensamos que esa ley hay que ponerla en valor porque pensamos que es una apuesta de pie en pared

también en este parlamento que supone como se dijo en una ocasión el sueño húmedo del capitalismo del siglo veintiuno que no es otra cosa

de explotación del siglo diecinueve donde las relaciones laborales no existen y por ende los derechos de las y los trabajadores no existen

precisamente para eso para despojar de todo tipo de derechos a las y los trabajadores y por lo tanto a nosotros nos parece que esa ley es una ley importante aunque efectivamente hay que hacer más cosas y creo que en el acuerdo al que se ha llegado se dice que hay que hacer más cosas se le dice al gobierno que hay que hacer más cosas y por lo tanto nosotros pensamos que es un buen acuerdo y como decía un acuerdo de avance en la defensa de los derechos de las y los trabajadoras para nosotros la prueba del algodón de que la ley rider

es en primer lugar ver la actitud que han tenido las empresas que sabíamos que estaban utilizando estos mecanismos para la explotación salvaje de las y los trabajadores

internas y externas primero durante la tramitación de la ley y posterior a la tramitación de la ley y como efectivamente también se ha dicho ahora abiertamente plantean y diseñan las estrategias para saltar la ley si esas empresas a las que yo como en otra ocasión vuelvo a llamar

fundamentalmente participadas por fondos de capital que lo único que buscan es la obtención de rédito a través no de la explotación de un negocio sino de la explotación de las personas estas empresas hay que señalarlas porque han venido presionando sobre la democracia para que no se legislase

y eso podía poner el principio para acabar con ese sueño húmedo de ese capitalismo de retorno al siglo diecinueve decía el señor

las plataformas no son ni buenas ni malas nadie ha dicho eso nunca en esta cámara no dice eso la iniciativa no dice eso creo que ninguna de las enmiendas presentadas

la tecnología y estas plataformas para buscar el despoje de los derechos de las y los trabajadores y contra eso había que actuar y se ha empezado a actuar decía usted también que se ha legislado tarde hombre yo le digo ya sé

también en este parlamento que se ha quedado usted solo pero creo que

en nuestro país hasta el año dos mil veintiuno donde el gobierno de españa ha legislado esta cuestión concreta sobre la que discutimos hoy o si no me equivoco la mayor parte del tiempo han gobernado sus compañeros

del partido popular nosotros pensamos que efectivamente compartimos

no acaba con esa ley y por eso saludábamos que se presentase esta iniciativa y pensamos que el acuerdo que se ha alcanzado es un avance por varias

señala a las empresas que puede parecer una cosa simbólica pero creemos que hay que señalarlas porque estas empresas son el verdadero enemigo son las que sacan

de la búsqueda de fórmulas de la explotación de las y los trabajadores en segundo lugar porque le dice al gobierno vasco

varias de estas empresas han empezado a acometer y que los sindicatos han empezado ya a denunciar que se persiga esa figura del falso autónomo

con el amparo de la nueva legislación vigente aunque previamente había sobradas sentencias de los tribunales también que así lo planteaban refuerzo de la inspección de trabajo porque para hacer esto hace falta reforzar

y la realización de campañas específicas destinadas a estos y a otros sectores donde también desde hace mucho tiempo de que existiera la economía colaborativa o llamada colaborativa

del falso autónomo y a través de otras fórmulas también de las falsas cooperativas los que venimos de trabajar en el mundo de transporte lo conocemos esto muy bien y en último lugar porque la iniciativa le insta al gobierno vasco también a que esté vigilante ante esas estrategias

el partido popular ciudadanos ya los hizo aquí también el señor damborenea cuando discutimos de esta cuestión no sé si fue en tiempos de la diputación permanente dicen hombre ustedes

las trabajadoras y los trabajadores tienen muchas veces muy difícil denunciar estas cosas y en este sector concreto mucho más

que actúen y que actúen en este caso se les pide yo para terminar

porque nos parece que efectivamente es un buen acuerdo nos parece que esa línea roja que han marcado

diálogo social que nosotros no teníamos ningún inconveniente tanto en recogerlo

como en no recogerlo si eso posibilitaba un acuerdo amplio nosotros desde luego no ponemos ningún inconveniente a ninguno de los dos planteamientos y también aceptamos que se vote por puntos para que varios de los puntos que introducen cuestiones importantes

de este parlamento porque de lo que se trataba hoy aquí era de que saliese una iniciativa del parlamento que avance en la defensa de los derechos de los trabajadores y sobre el último debate también simplemente una cosa sobre los modos de consumo

en lo que cobra el trabajador de telepizza no pensará usted

cada vez que llamamos le aseguro que pensamos en lo que cobra en cómo va a venir

el debate sobre la garantía de los derechos laborales de las personas que trabajan en la distribución en el ámbito de las plataformas digitales y se basa en las denuncias sobre la aplicación de la ley

en la confusión que plantea la sociedad y la continuidad de la vulneración de derechos laborales de forma sistemática y los socialistas vascos no compartimos ese diagnóstico que usted

creemos que la ley aprobada en mayo de dos mil veintiuno

por eso es importante la transacción que hemos conseguido con elkarrekin podemos izquierda unida porque pone en valor esa ley primero reconociendo

que modifica el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores eso es lo importante que los derechos se incluyen en el estatuto de los trabajadores para garantizar los derechos laborales de esas personas que se dedican al reparto en el ámbito de las plataformas digitales ese es el valor de la ley un valor contante constante y sonante

y por ley se determina la presunción de laboralidad de las personas trabajadoras que prestan esos servicios en las empresas de distribución

y se permite por ley el acceso de la representación de esas personas trabajadoras a las reglas de los algoritmos o de inteligencia artificial que pueden determinar o incidir

ni más ni menos y además rechazamos las presiones que se han ejercido por algunas de las empresas del sector como ya se ha comentado aquí tanto durante la tramitación de la ley como posteriormente a su aprobación y valoramos la enmienda de transacción porque previa a la aprobación de esta norma de esta ley los socialistas vascos consideramos

acuerdos de mayorías muy amplias respecto al debate que hoy nos han traído aquí euskal herria bildu y por eso lo hemos querido reflejar en la enmienda transaccional

en relación a las medidas frente a la precarización laboral y las repercusiones negativas que en los ámbitos de consumo se habían creado

y otro acuerdo importante que a ustedes se les olvidaba a euskal herria bildu se le olvidaba en su análisis y en su iniciativa y es el acuerdo de principios de mayo de dos mil veinte relativo

que se hace en la diputación permanente de este parlamento en plena pandemia del covid en dos mil veinte

puntos son cinco los acuerdos en tres de ellos se viene a decir que es necesario realizar acciones

evitar el fraude de las empresas con los falsos autónomos para evitar los abusos y garantizar prestaciones en caso de incapacidad y seguro médico y además se instaba

para acabar con el fraude de los falsos autónomos ese acuerdo es muy importante porque precede a lo que es la ley de riders

haya sido fruto del consenso logrado en la mesa de diálogo social

porque es así porque es la verdad esta ley de riders ha sido fruto del consenso logrado en la mesa de diálogo social

justas reivindicaciones de los trabajadores porque el texto

es un acuerdo al final ha alcanzado el diez de marzo de dos mil veintiuno

el real decreto ley se basa en ese acuerdo de la mesa de diálogo social del diez de marzo de dos mil veintiuno entre el gobierno de españa las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y es un acuerdo que lo que pretende es dar cobertura legal y proteger a las personas trabajadoras que prestan esos servicios

y de dirección empresarial distintas a las tradicionales también instamos en esa enmienda de transacción al gobierno a reforzar la actuación de la inspección de trabajo tal y como se recogía en la iniciativa que presentó elkarrekin podemos izquierda unida en diciembre de dos mil veinte para esa defensa del trabajo

el mantenimiento de las campañas específicas de inspección para luchar contra los falsos autónomos no solamente en el ámbito de los riders no solamente en el ámbito del reparto hay muchos sectores que están siendo objeto y ámbito

aplicación de falsos autónomos hablo del sector de la construcción hablo del sector forestal es decir que es mucho más amplio y contra eso hay que

y luego por último la enmienda de transacción es verdad que ante determinadas actitudes de algunas empresas lo que instamos es a que el gobierno esté vigilante sobre las estrategias empresariales

para todos aquellos que pretendan sortear la ley de riders y hacer fraude que en este sentido se pueden cometer por determinadas empresas que aquí ya se ha hablado miren en mayo de dos mil veinte la actual vicelehendakari idoia mendia reclamaba un nuevo estatuto de los trabajadores para incorporar los derechos

más servicios bajo nuevas fórmulas de economía y de todas las personas que desarrollan su labor fuera del centro de trabajo y los socialistas ni hemos considerado

que los avances tecnológicos que permiten nuevas formas de adquisición de productos o servicios o el desempeño de la actividad laboral se traduzcan en desigualdad

una nueva clasificación esa de consumidores empresas y trabajadores o trabajadoras de primera o de segunda porque no puede ser

un salto atrás en los derechos laborales y por eso de las primeras medidas que ha adoptado el gobierno de españa de pedro sánchez

está la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos para prevenir posibles fraudes de trasvases indebidos de trabajadores por cuenta ajena al régimen especial de trabajadores autónomos

de los falsos autónomos en junio de dos mil veinte los socialistas vascos también nos hacíamos una reflexión a través de la fundación ramón rubial y de la profesora sala de la rica

de trabajo que se habían hecho visibles durante el confinamiento el de las repartidoras y repartidores a domicilio de cualquier producto

eran nuevas realidades que exigían negociar un nuevo estatuto de los trabajadores

los derechos de los riders su desprotección y el fraude que acompañaba a la situación de muchos de ellos y las sentencias que aquí ya se ha comentado de los tribunales que reconocían su derecho a pertenecer

y aquí me detengo si las sentencias que se han emitido por parte de incluso del tribunal supremo han sido favorables

ha sido porque iban acompañadas de la mano de la inspección de trabajo del estado todas aquellas sentencias que se habían emitido en contra de esos derechos

no iban acompañados de la inspección de trabajo y eso ha sido un elemento clave

la sentencia que generaba doctrina por parte del tribunal supremo el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno por tanto para los socialistas vascos lo que nos importa es que se ponga en valor y que se califique de fundamental la incorporación de los derechos

que supone la aprobación de este real decreto ley y que ha resultado ha sido objeto de largos meses de negociación entre gobierno sindicatos y patronal muchos muchos meses esto no es un acuerdo de diez minutos

sea otro el que apechugue con el tema no no por eso es importante poner en valor el diálogo

y es verdad que ha habido por parte de las empresas también declaraciones contrapuestas la asociación de plataformas de servicio mostró su rechazo

sin embargo también hay empresas que han considerado que

de los repartidores y asegurar que todos los operadores del sector desarrollasen su actividad bajo las mismas reglas

ellos decían las plataformas digitales tenemos la responsabilidad de promover la creación de empleo legal seguro y de calidad en nuestro país pues es una declaración

que pretenden superar y enfrentarse a los derechos de las personas trabajadoras respecto a bildu yo lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo nuestro desencuentro se ha centrado es verdad

social en su negativa a que se introdujera en el texto como si el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno en esa mesa de diálogo social

hoy podemos disponer de una ley y mire señora

para los socialistas no hay instrumentos más eficaces para respetar los derechos de las personas que hacer cumplir la ley con los instrumentos que la administración tiene en su mano como hace

que esos falsos autónomos es un hecho que supera con creces el ámbito de las empresas de distribución a través de plataformas digitales y tan solo un comentario

no estábamos de acuerdo en el primer punto entendemos que la estrategia vasca por el empleo de dos mil treinta que se debatió en comisión en su resolución número siete plantea claramente cuál es la posición del parlamento y del gobierno vasco respecto

colaborativa y el segundo punto entendíamos que estaba mucho mejor recogido en nuestro tercer punto de la enmienda de ahí que no hayamos llegado

itxite eta nik uste dot hori dela gaurko gaiaren oinarrie como decía este debate no es nuevo

acuerdos aprobados con amplias mayorías que hemos querido poner en valor en la enmienda transaccional que hemos firmado acuerdos que tienen como base el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras denominadas riders y que se dedican al reparto en el ámbito de las plataformas digitales sector que dicho sea de paso tanto nos ha ayudado en época de confinamiento

abastecernos pero desde la última vez que se debatió y se acordó dar apoyo desde esta cámara al reconocimiento de los derechos de las personas riders se ha dado un paso más disponemos en estos momentos como ya se ha comentado de la denominada

entre patronal y sindicatos dando respuesta a lo que consideramos unas justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de este sector esta normativa entró en vigor el trece de agosto de dos mil veintiuno hace menos de dos meses

quienes hasta ahora ostentaban la figura de falsos autónomos y autónomas

pero eso lo damos por hecho ya que el proceder de la inspección de trabajo consideramos que

que la legislación laboral se cumpla y estar vigilante sobre el fraude que en ese sentido puedan cometer dichas empresas con lo cual no le vemos sentido a que pidamos medidas complementarias en este momento u otro tipo de herramientas a una ley que lleva en vigor menos de dos meses

behintzat egin du con lo cual yo creo que nuestro deber tiene que ser el de por una parte

de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales por otro lado poner en valor también como ya he dicho los amplios acuerdos

a estos trabajadores y trabajadoras y continuar avanzando en las campañas de sensibilización en contra de estos falsos

como he dicho que en este sentido puedan cometer determinadas empresas y así tal cual es lo que hemos plasmado en nuestra enmienda transaccional amaituteko nik uste dut

he dicho antes es lo que han dicho los riders mediante sus declaraciones han dicho claramente que se les ha desinstalado la aplicación después de que se haya aplicado esta ley que les dieron a elegir algunas empresas

seguir siendo autónomos falsos autónomos o si querían

eso no es aplicar la ley estaban esquivando la ley y eso es una realidad que se ha dicho muchísimas veces y que lo han denunciado varias plataformas y varios

al diálogo social y a la mesa de diálogo social yo creo que en estos momentos

se ha confundido o por lo menos a mí me ha dado la sensación de que se confunde

a la mesa de diálogo social hemos venido diciendo y hemos dicho y usted también lo ha repetido no estamos ante una ley que se haya solucionado o decidido solamente en la mesa de diálogo social ya que hay unas reuniones que la preceden existen unas conversaciones existe una lucha de los riders muy potente que se ha llevado a cabo en todo el estado español

hecho hincapié en que sus derechos laborales tienen que ser dignos y tomados en cuenta por lo tanto

como se recoge en la transaccional se dice la llamada ley de riders haya nacido del consenso logrado de la mesa de diálogo social creo que no se puede decir que haya nacido solo del consenso de la mesa de diálogo social y es ahí donde nosotras

podemos estar de acuerdo en el tercer punto por lo demás ados gaude gainontzeko puntuetan guk ere jatorrizko proposamenean

saez de egilaz andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria bertatik desde

nada solamente un minuto para insistir en que no es bueno que generalicemos y demonicemos a todas las empresas porque simplemente es profundamente injusto dice el señor hernández que en ningún sitio dice que todas las empresas sean buenas o malas pero luego él las llama así en genérico piratas

que particularicemos y que seamos justos con quien cumple la ley y con quien no cumple la ley y por último aclarar que cuando me refería

me estaba refiriendo en genérico a la conducta de los consumidores no a la mía estoy seguro de que en su caso estoy seguro de que es famoso por las generosas propinas que les deja pero

la conducta en general de todos muchas gracias eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

importante yo desde luego le reconozco a la proponente que es un tema importante

nuestro grupo saluda que en días como hoy se traigan iniciativas sobre los derechos de los trabajadores así lo hemos hecho también nosotros en otras ocasiones tiene razón

ya se están buscando las estrategias para saltar las normas eso es verdad eso lo estamos viendo y los sindicatos ya están también en marcha

la lucha no acaba ni con ese real decreto ni acaba con esta iniciativa de hoy eso está claro porque la lucha de clases y la lucha por los derechos de los trabajadores desde luego

recoge cosas que son un avance importante y que es positivo que el parlamento

y no que hubiera habido un acuerdo y nos hubiéramos quedado con la iniciativa original de los grupos que sostienen al gobierno

yo creo que con lo que se ha acordado se avanza mucho más porque sí le décimos al gobierno que tiene que hacer cosas se dice que hay algunas cosas sobre el control a la ley que va de suyo que se entiende que el gobierno tiene que hacerlo pero se lo pedimos

y se lo pide por una razón más allá de la valoración que podamos tener cada uno de los grupos

de la inspección de trabajo sobre la dimensión de las diferentes herramientas para luchar contra esta injusticia sino sobre todo porque corroboramos que ahora mismo

de esa ley hay empresas que siguen diseñando estrategias para saltárselas y para seguir explotando a las y los trabajadores contra la ley

que es importante señalarlo y señalarlas decía el señor gil vegas es malo generalizar

tanto que no hemos generalizado que le hemos puesto los nombres a las empresas a glovo a deliveroo

porque lo hacemos con pruebas porque sabemos lo que están haciendo estas empresas

no se las señala pero se dice determinadas empresas porque efectivamente

que tal vez no tengan esas prácticas pero ha habido unas muy concretas importantes empresas con mucho capital detrás que están haciendo esas prácticas de presión y hemos visto las actuaciones de glovo hasta el punto de decir que abandona la ceoe porque se estaba llegando a un acuerdo

que se va por qué porque no está dispuesto a respetar los derechos de las y los trabajadores y a algunos les escandaliza algunas expresiones de mis compañeros de coalición en madrid cuando dijeron pues agur pues sí porque a ese tipo de empresas

que agur porque efectivamente no queremos empresas que se fundamenten en la explotación salvaje de las personas sin ningún tipo de derecho laboral y eso no es generalizar contra las empresas y me parece importante señalarlo porque usted lo dice dice que generalizamos de esa manera

espero que se vote por puntos creo que todos hemos explicitado que sí a la votación por puntos y creo que va a salir un buen mensaje del parlamento una vez más en defensa

vamos a ver señora saez de egilaz es verdad yo le agradezco que haya traído aquí

decente pero en este parlamento y el gobierno vasco y el gobierno de españa no ha trabajado

sobre el trabajo decente hoy llevamos plenos acuerdos parlamentarios acuerdos del gobierno de españa acuerdos del consejo de ministros acuerdos del congreso de diputados todos los que usted quiera sobre el tema del trabajo decente y cómo hacer valer

en el empleo la mayor muestra de ella se ha sido capaz de transformar un problema

los trabajadores de las empresas de distribución de plataformas digitales se ha conseguido transformar en artículos de la ley del estatuto de los trabajadores dar amparo legal dar amparo legal y si yo insisto en la mesa de diálogo social

desde el ministerio de trabajo y economía social se dice

el real decreto ley da rango legal al acuerdo alcanzado el diez de marzo entre el ministerio de trabajo y economía social las organizaciones sindicales y empresariales en una mesa

el tema del diálogo social yo no le he pillado dónde realmente tiene usted el problema excepto que los riders o algunos de los riders pueden entender que su presión en la calle no ha sido

pero mire para los socialistas vascos el diálogo social es una herramienta clave para conseguir el amparo de los derechos y otra serie de condiciones de las personas trabajadoras en españa en europa en el mundo en el mundo porque no podemos olvidar que

comprende todo tipo de negociación consulta o simplemente intercambio de información entre las personas representantes de los gobiernos y considera que el diálogo social

así como la justicia social y desempeña un papel crucial para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y conseguir un trabajo de calidad

seguridad y dignidad y creo que por eso en el programa de gobierno que tenemos en euskadi

importante y clave en el acuerdo de gobierno y en el programa de gobierno y es el compromiso para profundizar en el diálogo social con iniciativas

el tema del diálogo social con alfileres nosotros creemos en el diálogo social si ustedes no tienen un problema tienen un problema

porque no sé quién dice que no se ve reconocido en un acuerdo ya pero es que para un acuerdo para llegar a un acuerdo hay que dejarse pelos en la gatera

ni siquiera el propio ministerio estarían de acuerdo en el cien por ciento de lo que se recogía en ese acuerdo claro porque tenían más reivindicaciones

los acuerdos en dejarse pelos en la gatera y sabe qué es lo que lamento

a echar en cara a bildu de que o es lo suyo o no es y así no no joe no

o se juega con bildu a todo lo que plantean o no se juega y eso no puede ser

porque nunca llegaremos entonces a acuerdos y yo lo lamento porque tan solo el tema de mesa de diálogo social ha sido el problemón para no llegar hoy al mismo acuerdo que tenemos hoy con elkarrekin podemos izquierda unida

la disposición y los mensajes que nos hemos intercalado por tanto yo sí creo que hay un compromiso claro del gobierno de españa del gobierno de euskadi por seguir manteniendo la calidad en el empleo por empleos dignos por empleos decentes y creo además que ustedes decían

se hace mucha apología pero luego no hay compromisos pues para no haber compromisos ya hay planes eh ya hay planes en euskadi el plan berpiztu

el gobierno de españa diez asuntos diez asuntos claves ha sacado adelante el incremento del salario mínimo interprofesional cinco acuerdos sociales en defensa del empleo acuerdo por la reactivación económica del empleo regulación del trabajo a distancia

caramba ya se sacan acuerdos adelante lamento de verdad

de acordar por el término mesa de diálogo social ese ha sido el único problema me parece muy grave en un día como hoy eskerrik asko

de una manera el uno y el cuatro de otra manera el dos y el cinco y de otra manera el tres
el tres vale beraz

itxoin itxoin carmelo bai barrio jauna por lo tanto vamos a ver

conjuntamente dos y cinco conjuntamente y la tres

tres grupos uno cuatro dos cinco y tres ondo